muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señores consejeros señoras consejeras señorías las cosas

de política general del año pasado y han cambiado a peor son ahora muchas las dudas y pocas las convicciones en torno al escenario político de los próximos meses

nuevo en españa que parece que está sumergido en una complicada interinidad no solo porque tiene muy pocos parlamentarios sino porque depende de fuerzas políticas de todo tipo donde hay populistas y radicales y porque muestra una preocupante falta de orientación

a improvisar y rectificar a diario un gobierno que fía su continuidad

y sustentan su discurso político en el cuestionamiento de nuestra democracia y nuestro régimen de derechos y libertades estos son los aliados de pedro sánchez en un viaje sin destino conocido pero amparado en su inicio por un frente común

y al partido popular estamos ante un gobierno en fase de laboratorio

en los problemas de los ciudadanos a veces es peor

imposible de sostener los ejemplos más evidentes han sido los bandazos en política migratoria donde hemos pasado del buenismo mal entendido al choque con la realidad o la falta de reacción y tardía defensa ante un nuevo ataque a nuestro estado de derecho nuestro orden jurisdiccional

en ambos casos subyace un preocupante déficit en el rigor y la prudencia

a cualquier gobierno serio pero también el alto precio de mantener apaciguados

el resultado es un gobierno en precario que en solo cien días ya ha visto la dimisión de dos ministros

las fuerzas que lo hicieron posible andan con mucha prisa por pasar la factura las cosas no han cambiado solas las han cambiado ustedes

una mayoría que les agrupa a todos ustedes para excluir al partido popular es el gobierno que querían la consecuencia de la política de alianzas de su partido señor lehendakari hasta esta mañana podíamos albergar alguna duda sobre las intenciones del pnv al apoyar al gobierno de pedro sánchez usted las ha despejado con una contundencia inusual en su estilo político y que nos causa

porque usted ha venido esta mañana al parlamento con un objetivo fundamental exigir a sánchez el precio político de su apoyo a la moción de censura

y distorsiones de la historia capítulo de falsedades

no es cierto que existan treinta y siete competencias sin transferir el documento de su gobierno no resiste un análisis con algo de rigor

y aeropuertos es que para que se cumpla el estatuto el puerto de bilbao o el aeropuerto de loiu tienen que dejar de ser de interés general

al margen de cualquier previsión del estatuto qué es para ustedes completar el estatuto

si queda alguna competencia sin transferir es únicamente porque ustedes no la quieren más que de boquilla como es el caso de las prisiones o la rechazan con los únicos términos en que es posible que es el de

como es el caso de la seguridad social igual hicieron con las políticas activas de empleo y las tuvo que acordar un lehendakari socialista

por qué no explica señor urkullu que las instituciones vascas gestionan competencias que no estaban previstas en el estatuto le daré una muestra dónde pone en el estatuto

la realidad es que no existe ni en bélgica ni en el reino unido ni en suiza que son los países que este año nos ha traído como novedad una región con tanto margen de autogobierno como el país vasco según falsedad el modelo de la europa confederal que es su inspiración

es una unión de estados soberanos con normas de armonización por cierto que ustedes rechazarían para el estado fíjese se aprueban directivas en europa que son de obligado complimiento para los estado miembros al margen de las competencias obligan a cambiar las leyes y no prevén el pase foral

nos ha hablado reiteradamente de su documento una visión para europa yo tengo una pregunta

le ha dado la razón van a preparar un proyecto de directiva de claridad como pretendía usted

con el beneplácito de la unión no verdad pues mejor no confunda a los vascos pintándoles como posible un futuro que usted sabe que es absolutamente ilusorio le parece tan fácil romper un país no ve las dificultades que tiene nada menos que el reino unido que no es un país menor tiene hasta derecho de veto en naciones unidas para salirse de la unión

responsable frivolizar con estas cuestiones distorsiones de la historia verá en mil ochocientos treinta y nueve y mil ochocientos setenta y seis

no existía como entidad jurídica o política no le pudieron arrebatar nada

que son las titulares según la constitución de los derechos históricos a navarra sí pero los navarros negociaron y aprobaron su ley paccionada en mil ochocientos cuarenta y uno permitiendo que sus libertades forales se acomodaran al nuevo estado liberal porque lo que se quería era construir un estado liberal moderno ya sabe igualdad ante la ley

a dónde nos quiere llevar usted no existe un país vasco idílico previo a mil ochocientos treinta y nueve

desigual y agobiada de privilegios no podemos regresar a eso en nombre de supuestos derechos de la historia los derechos históricos no son lo que usted pretende argumentan ustedes también de manera interesada al igual que los separatistas catalanes

en sujeto jurídico político en virtud de los derechos históricos recogidos en la disposición adicional primera de la constitución olvidando precisamente

sino el poder constituyente el que otorga validez y vigencia a esos derechos y que constitucional y legalmente no existe más sujeto soberano que el pueblo español en su conjunto

pero la lealtad es una palabra que a su partido le viene grande porque solo les vale lo suyo su apuesta es una apuesta por la unilateralidad pongamos por caso

y necesitan armonizarse cómo va a ser eso posible si el principio de legalidad es consecuencia del principio democrático la democracia se expresa en leyes y consiste también en cumplir las leyes iguales para todos qué es para usted el principio democrático

ya no rijan las leyes sino su voluntad cuál es la concepción nacionalista de la democracia

de democracia plurinacional eso que es una democracia de naciones no somos ya una democracia de ciudadanos de ciudadanos lehendakari

sin que eso pueda menoscabar sus derechos se ha fijado en la distinción

de su nuevo estatus unos vascos serán nacionales y otros pues seremos vecinos y habrá un censo que nos señale

y lleva a la unilateralidad al órdago y a la amenaza ha exigido esta mañana un doble sí

al margen de lo que haya considerado el tribunal constitucional o de cualquier otra interpretación

el emplazamiento naturalmente no era ya para nosotros los del pp a nosotros por lo que hemos visto hoy ya nos dan por amortizados a lo que se ve ya no podían sacar más del pp y rajoy era un obstáculo han puesto al frente de españa al gobierno más débil de la democracia y ahora le dicen que o cumple esas exigencias o que se atenga a las consecuencias

fíjense a nosotros el último acuerdo con el pnv nos duró una semana

qué es eso de qué otra alternativa nos queda eso es una amenaza al estado eso es cataluña

si no se atienden sus exigencias es verdad que el gobierno de sánchez deambula una necesidad grande

nada podrán hacer sin su apoyo porque para todo eso les necesitan a ustedes pero yo me pregunto

por qué no va a ser capaz con la misma coherencia de dejar caer sin presupuestos al gobierno que ha embestido este es un juego de regate corto para engañar a todos

ni cargar con las consecuencias de sus actos lamento constatar señor lehendakari que su discurso de hoy no solo me ha preocupado también me ha decepcionado

en el tono aburrido de un consejero delegado parecía una reunión de directores del gobierno vasco

se diría que para usted euskadi y los vascos somos una estadística lamento no poder detenerme hoy con más detalle en algunas cuestión pero tiempo nos dará

menores su balance de mitad de legislatura por decirlo de una manera amable es francamente mejorable tomemos por caso

de los veintiocho proyectos de ley previstos al margen de los dos presupuestarios apenas se han aprobado tres dos de ellos venían además de la legislatura anterior

las proposiciones de ley no las cuento porque está feo adueñarse del trabajo de otros

y con tan magro resultado viene usted hoy a la cámara y nos promete más leyes entre otras la de aportaciones que son incapaces de pactar ustedes con ustedes mismos sinceramente qué fatiga para su grupo parlamentario porque esperar

por tanto en leyes suspenso señor urkullu y no por falta de apoyo porque nosotros hemos aprobado las tres qué decir de las reformas

lamentablemente cada año hacemos el mismo diagnóstico porque cada año pasa prácticamente en blanco sin cambios relevantes

más optimistas cierto que este año se ha mostrado algo más crítico con la realidad pero sin pasarse reconoce problemas con la natalidad el emprendizaje la calidad de empleo la situación de la juventud la gestión de las ayudas sociales o la limpieza en las oposiciones de osakidetza

porque a reglón seguido y sin ruborizarse ha señalado la existencia de un cambio positivo en educación hay que tener cuajo señor lehendakari le recordaré algunos datos difíciles de olvidar sobre nuestro sistema educativo

con estruendosos suspensos en ciencias matemáticas o lectura todas las evaluaciones previas alertaban ya una tendencia negativa pero su gobierno siguió mirando hacia otro lado eludiendo la responsabilidad y sin tomar medidas

en diciembre del año pasado por ejemplo nos llegó otro resultado demoledor esta vez en comprensión lectora sabía usted

donde más se nota la diferencia de resultados según la titularidad pública o concertada de los centros los públicos por cierto son los que usted gestiona directamente también en noviembre

referido al trabajo en equipo de los alumnos vascos para resolver problemas

llegaron los resultados de la evaluación diagnóstica del diecisiete que vinieron a confirmar el fracaso de nuestro sistema educativo los escolares de primaria retroceden en todas las materias

euskera e inglés además de empeorar en castellanos y estancarse en ciencias

desde dos mil nueve en matemáticas ciencias y euskera se estancan en castellano y mejoran en inglés posiblemente porque el noventa y uno por ciento del alumnado de la eso hace extraescolares en ese

especialmente llamativos son los resultados en euskera donde desciende el nivel de euskera en las aulas y ya suspende uno de cada tres alumnos a mí me ha resultado

el treinta por ciento de los alumnos no supera el nivel inicial de destreza hablada y escrita y solo seis de cada diez dominan el euskera al acabar su formación obligatoria algo no se está haciendo bien señor urkullu cuando a medida que se incrementan las horas de euskera en las aulas empeoran los resultados en dominio de la lengua vasca en suma a pesar de crear un modelo cautivo de la inmersión lingüística los resultados se estrellan hasta en euskera esta es la realidad señor urkullu pero mientras tanto la reforma educativa sigue esperando en esta materia educativa cuando damos los datos usted siempre responde ofreciendo un pacto

y no sabe cómo afrontarlo ofrece un pacto hoy lo ha hecho con la inmigración

señor lehendakari el otro día conocimos a través de un estudio de lanbide

que son los jóvenes precisamente uno de los sectores más perjudicados por la crisis económica sufren importantes índices de temporalidad cincuenta y cinco coma cuatro de los contratos son a tiempo parcial y precariedad

muchos de ellos deciden hacer las maletas y viajan a otros sitios con mejores expectativas laborales ante la falta de medidas de su gobierno para retener el talento si a ello sumamos el problema de envejecimiento que padece euskadi que desde el dos mil siete ha reducido su población

vemos que efectivamente como ha presumido usted se dispara el gasto en sanidad y en servicios sociales

que no se pueden emancipar por problemas económicos le preocupa el dato

ha pensado en algo que funcione para ayudarles o también se tendrán que marchar

el dato del quince por ciento de paro juvenil que ha dado usted de dónde se lo han sacado porque el eustat que algo tiene que ver con ustedes da el veinte coma siete

da el veintiséis coma dos es mucho más pesimista a

pregunte por ahí y acláramelo no vaya a ser yo el que está equivocado

con este tipo de datos para que no lo pase usted mal yo le quiero menos que a su gobierno porque usted no se deja

ante la falta de reacción y la pasividad en políticas que favorezcan por ejemplo un mayor apoyo a jóvenes emprendedores para el gobierno vasco el emprendizaje no es una prioridad

en una política intervencionista de control que en aquella que fomenta y alienta la iniciativa personal por eso creo que euskadi necesita un impulso liberal ya sé que esa palabra suena rara en esta cámara pero necesita un impulso liberal un cambio de mentalidad

que conceda mayor protagonismo y poder a las personas lo mismo puede afirmarse del reto demográfico han incumplido los compromisos recogidos en el tercer plan de familia especialmente los incrementos por las ayudas por nacimiento

y han incumplido también la inversión plurianual de doscientos millónes de euros para los próximos cuatro años tampoco el aumento de las prestaciones por segundo hijo de dos a tres años parece suficiente para atajar de forma decidida un problema que afecta a la columna vertebral de nuestra sociedad y yo creo que el tema

y que hay un problema mucho más de fondo pero creo que este es uno de los retos de futuro esenciales y que usted debería prestarle la máxima atención y en esta cámara también prestarle atención

la solidaridad de los vascos no está en cuestión y forma parte de nuestras señas de identidad pero nuestro sistema social no está a la altura de las exigencias de esta sociedad ni de los objetivos que se propone y su fracaso se prolonga en el tiempo sin que en los últimos ejercicios apreciemos síntomas de recuperación han sido incapaces de abordar una reforma en profundidad del servicio vasco de empleo de adoptar las medidas necesarias para mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas

la nefasta gestión de las ayudas sociales la propuesta que han traído aquí los grupos que le respaldan y que no tuvo apoyos es insuficiente y confusa

presenta lagunas incomprensibles en la regulación de aspectos esenciales no resuelve carencias en los requisitos de acceso a las ayudas no incorpora instrumentos efectivos de control

desde el partido popular entendemos que el modelo que funciona yo se lo he oído decir a usted pero luego los hechos no concuerdan

hacia el mercado de trabajo y el que realiza una gestión eficaz de las prestaciones eliminando las situaciones de abuso o de fraude

la corresponsabilidad y la sostenibilidad deberán traer de nuevo la reforma a esta cámara pero tendrá que haber cambios importantes si quieren recabar los apoyos necesarios hacia dónde inclinen esos cambios determinará el socio que quieren para sacar adelante esta ley

que tendrán que elegir porque será imposible satisfacer nuestras expectativas al mismo tiempo que las de bildu o las de podemos

señor urkullu la debilidad política del gobierno de pedro sánchez que es el suyo

algunos indicadores económicos ofrecen los primeros síntomas de desaceleración en el crecimiento

la ralentización de las exportaciones o la pérdida de fuelle en el consumo de las familias también en el país vasco se empieza a acusar el retroceso

pero euskadi ha tenido un incremento en el número de parados en el mes de agosto superior al nacional será por el turismo aquí

me dirá que ya están a punto y nos lo ha dicho esta mañana de conseguir su objetivo de reducir la tasa de paro

no podía celebrarse eso como una cosa de gran mérito porque era solo cuestión de tiempo no había que hacer nada es otro de los datos que ha dado usted para que esté contento dice no vas a conseguir esto claro de listo en bajito para poder saltar sin dificultad le puedo dar otros datos fíjese

hay más de un millón de afiliados nuevos a la seguridad social conjunto de españa de esos euskadi ha aportado once mil el uno por ciento no

pero en ese mismo período de tiempo sabe cuántos pensionistas nuevos hay en el país vasco trece mil quinientos

pero lo que estamos haciendo no es aumentar nuestra población activa que trabaja sino que nuestra población ocupada

se ha incrementado en un ritmo menor que el número de nuestros pensionistas le diré más en los ocho primeros meses de dos mil dieciocho

han sido indefinidos en el conjunto de españa está por encima del diez por ciento además el sector industrial que es el nuestro que es la referencia de la economía vasca

en el último año ha disminuido su empleo en dos coma tres por ciento en el país vasco en el conjunto de españa se ha incrementado en un tres coma veintisiete por ciento cómo va a afectar

esa política errática entorno al diesel a la principal empresa del país vasco y a todo nuestro sector de automoción ahora dicen que sánchez

que ustedes todavía no han denunciado que yo sepa para abordar una mejora de la fiscalidad de las familias y de las rentas medias y bajas el año que viene es decir bajar los impuestos bajar el impuesto de la renta y devolver a los ciudadanos el esfuerzo que realizaron durante la crisis

por encima del diez por ciento comprenderá y quiero dejarlo claro que la moderación de la política fiscal es condición para cualquier entendimiento con nosotros en materia económica

señor lehendakari usted no se ha referido a eso y tampoco nos ha dado las gracias pero nosotros hemos colaborado estos dos años con su gobierno a cambio de estabilidad moderación y reformas ese era el acuerdo

pero me ha dejado colgado usted a mí hoy sabemos que la moderación era un recurso en su lenguaje

con su incapacidad para tomar decisiones y tomar partido no pueden cambiar nada porque son incapaces de elegir

y en todos los ámbitos de reforma y no reforma manejan un doble discurso que lógicamente les termina llevando a la parálisis

a una política de calado en euskadi que atienda las necesidades sociales y los retos de futuro

por qué no deja a un lado sus intereses electorales el permanente afán de poder de su partido y actúa pensando en cómo fomentar una euskadi que crezca y cree oportunidades

y no convierta a los ciudadanos en rehenes de sus obsesiones soberanistas

señor urkullu eta no está ya

que se revelara contra su proyecto de construcción identitaria y se despidió ustedes estuvieron allí

y el independentismo de izquierdas su último comunicado decía literalmente materializar el derecho de elegir para lograr el reconocimiento nacional será clave

a la constitución del estado vasco esta encomienda política es la que guía los pasos de bildu pero también la que les arrastra a ustedes las bases acordadas con la izquierda abertzale

y usted dijo que la iba a evitar acumulación de fuerzas independentistas

de los que no son nacionalistas voy terminando señor lehendakari de un paso atrás rectifique

no nos lleve por el camino de división inestabilidad política y empobrecimiento económico le pido responsabilidad y sensatez

por una convivencia plural en la que nadie pueda ser nunca considerado ciudadano de segunda por tener una ideología determinada

al país vasco yo lo hago desde mi posición de partido que durante dos años ha proporcionado estabilidad desde la legitimidad de haber favorecido acuerdos porque creíamos

en la que todos podemos aportar porque nos creemos una comunidad moderna plural y dinámica motor de transformación también dentro de españa

y como le dije en la última sesión de control ya no me quedan motivos para confiar en usted

pone en juego la estabilidad se aleja de las reformas que necesita euskadi

porque cuando ustedes miran a españa piensan en cómo obtener réditos de su debilidad y cuando gobiernan en euskadi se manifiestan como el partido más reincidente en proyectos excluyentes y perjudiciales para los vascos perfectamente calculados para mantener su maquinaria de poder

dos años de oportunidades con mayoría ha desperdiciado las oportunidades y ha despreciado sus apoyos hoy puede pensar que tiene más amigos que antes

y ha acordado también con podemos en madrid y con los separatistas de cataluña que tanto les inspiran puede que alguno de ellos les saque este año los presupuestos si es así será malo para los vascos y para usted pero le aseguro dos años

si lo quiere evitar tiene que enmendarse a fondo porque ya no basta con las palabras no es posible engañar a todos todo el tiempo ni siquiera es posible para usted

supongo que en su cambio de socio se siente ya ensanchado que nosotros no tenemos tantos parlamentarios como eh bildu su política de ensanchamiento se reduce a que los demás nos sumemos a sus pactos con bildu o no se reduce a eso

y al referéndum que llaman consulta habilitante reconocerá la soberanía del pueblo español o nos quiere obligar en aras del ensanche a privar de sus derechos políticos a la mayoría de los españoles yo no sé si le van a respetar el acuerdo a bildu yo que ellos también me lo hacía mirar con notario

tampoco respeta el propio acuerdo de esta cámara cuando se constituyó la ponencia

tampoco eso se ha cumplido de qué vale la palabra de qué vale su palabra

del pueblo señoría traeremos a este pleno una proposición para desbaratar este entuerto sus palabras vienen a veces edulcoradas

otras como hoy en tono más amenazante que se vaya mirando sánchez

sinceramente si aspira a ganar nuestra confianza para algo queremos hechos

y la realidad nos dice por desgracia que en tozudamente los hechos

que su aspiración era que todo aquel que viviera en nuestro país hubiera nacido o no en él

de participar en la responsabilidades del gobierno la voluntad de acordar

y de sacar adelante proyectos que benefician al conjunto del país ese tan arraigado en nuestra tierra puesto al servicio del conjunto de la ciudadanía y quería empezar mi intervención con esta referencia

este importante aniversario este año se han cumplido cuarenta desde la constitución del consejo general vasco un órgano que no se dedicaba solo a gestionar

que estaba liderado por rubial y que tenía el reto de reconstruir la convivencia y hacer de esta el motor de la transformación de euskadi era un equipo destinado a consolidar la cultura política nacida cuatro décadas antes y quebrada por la guerra y la dictadura

y su posterior desarrollo la que permitió la etapa de mayor progreso y cohesión social en euskadi y debemos tener bien aprendido

solo se construyen desde el reconocimiento mutuo desde la asunción de las diferencias desde el respeto a la legalidad desde los principios de la libertad la igualdad la justicia y la solidaridad

las ganas que seguimos teniendo los socialistas las que compartimos con la mayoría de los ciudadanos

el socialismo vasco no va a dimitir nunca de esa voluntad de esa aspiración a la suma de esa ambición de transformación de esas ganas de construir el país juntos

abdicar de su responsabilidad con la ciudadanía vasca de garantizarle un camino seguro un camino que requiere sosiego y valentía legalidad y ambición por eso en este curso que empieza el grupo socialista va a seguir comprometido en explorar las muchas coincidencias que tenemos con todos los grupos en saber administrar las diferencias también y en saber entender

vamos a explorar a fondo el camino que la existencia de eta bloqueo el de la convivencia plena

en una sociedad diversa porque lo necesitamos porque es nuestra gran asignatura pendiente y porque de conseguirlo será el aldabonazo definitivo

esa cultura y la mejor de nuestras tradiciones el acuerdo entre diferentes para progresar de la mano sin que nadie ni una sola persona se sienta excluida de ese proyecto compartido ese es el compromiso nuclear que pretendo trasladar a este debate por parte de mi grupo

en la búsqueda de los acuerdos lehendakari le he oído también esta mañana apelar usted al acuerdo sabe que fue el motor del pacto que alcanzamos hace casi dos años para que el gobierno que preside en el que participamos los socialistas se centre en el empleo en la igualdad en los derechos sociales

públicos y en preparar a euskadi ante los grandes retos y también para buscar un nuevo proyecto de convivencia

que garantizara la pluralidad y que se hiciera dentro del ordenamiento jurídico vigente que lo íbamos a buscar aquí en euskadi en esos términos y le reitero el compromiso es socialista sincero y leal para lograr ese objetivo es un compromiso adquirido con en el conjunto de la sociedad vasca por eso participamos en el ejecutivo

todavía no se ha conseguido ese acuerdo entre los partidos es lo primero que debemos de ser capaces de constatar en lugar de arrojar la pelota a la responsabilidad de otros tejados

tenemos que conseguirlo aquí entre nosotras y nosotros porque si de verdad asumimos que estamos en una sociedad muy plural como creemos los socialistas de lo que se trata es de integrar las distintas formas de sentirnos vascos y eso de momento no se ha hecho ha reconocido la actitud del nuevo gobierno de españa que escucha a las personas y a los territorios en un mes

asuntos atascados en los tribunales en un mes había creado por primera vez una comisión permanente de dialogo y encuentro entre ambos gobiernos pero no es responsabilidad del presidente pedro sánchez arreglar aquí lo que no sepamos encauzar

de poco sirve invitar al acuerdo si hoy ya se nos da por cerrado un modelo de poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece solo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad usted defiende un modelo confederal

estamos en un modelo autonómico que solo podemos cambiar si reformamos la constitución si no es así y lo sabe usted lo que ahora plantea

y quiero reiterarle el grupo socialista seguirá comprometido en aquello que firmamos para la gobernabilidad de este país y seguiremos comprometidos sobre todo

que tanto nos enriquece que tanto nos ha costado preservar y que se plasma en la vía de los amplios consensos porque un curso político en el que volverán las citas con las urnas y aquí en este parlamento va a haber mucha tentación de pensar más en algún voto que se pueda arañar

en los próximos meses seguirá buscando conciliar voluntades sobre los mínimos que suman a toda la sociedad para impedir que los máximos de una parte de esa sociedad

existe un enorme cauce en el que cabemos todos y es el que hemos trabajado y seguiremos empeñados en trabajar porque la búsqueda de acuerdos no responde por nuestra parte

de oportunidades y de responsabilidades de todos y cada uno de los grupos para que los problemas no se pudran para encontrar soluciones porque para eso y no para ninguna otra cosa estamos aquí para eso sirve la política y no solo hablamos de transferencias pendientes o de desanudar cuestiones atascadas tras la desaparición de eta

que no son la agenda exclusivamente vasca pero que nos afectan directamente también a todos y cada uno de los vascos y vascas porque nos concierne ir corrigiendo los desmanes en los derechos laborales los desmanes en la protección del derecho a la salud los desmanes en la garantía en la igualdad plena de las mujeres los desmanes que han puesto en peligro a la sostenibilidad de las pensiones públicas dignas hay en esta cámara

decisiones del gobierno de españa pero no es una cuestión de preferencias es una cuestión de realidad de las realidades que viven las personas a las que hemos acompañado en las calles

de esas realidades queremos hablar hoy y de esas realidades es donde constatamos que es mucho más

y sobre lo que nos une es sobre lo que queremos volcar todos los esfuerzos nos une nuestra voluntad decidida de recuperar de una vez a la mitad de la población que las mujeres se sitúen en pie de igualdad en todos los ámbitos políticos económicos y sociales que el socialismo vasco se comprometió en campaña a sacar a la mujer del rincón de la protección y ubicarla en la cabina de mando por razones de igualdad pero también porque es un inmenso capital que euskadi no se puede permitir desperdiciar

allí estábamos apenas dos semanas después estábamos también aquí en el acuerdo con el resto de los grupos en torno al pacto de apoyo

una de nuestras prioridades en este mandato una propuesta renovadora que supera las políticas natalistas asistencialistas y paternalistas porque las mujeres no demandamos protección demandamos nuestro derecho

sola o acompañada nos suponga una condena por eso era tan importante extender los permisos de parentalidad euskadi fue pionera

para seguir levantando las barreras que nos impiden ser iguales como tenemos que elevar la exigencia que también nos une contra el intolerable intento de sumisión de la mujer

haber sido pioneros en europa con una ley integral de protección tenemos que actuar sin matices desde cada instancia desde cada casa desde cada administración pública

para que todas las mujeres nos podamos sentir plenamente libres y también en relación a la mujer nos queda acortar la brecha salarial los últimos datos que conocemos

la discriminación salarial por ser mujer está prohibida en españa pero ellas siguen accediendo a empleos de peor calidad y eso acaba condicionando sus ingresos

a esa situación es lo que tiene sobre la mesa el departamento de trabajo una batería de actuaciones concretas y evaluables medidas tasadas contra el fraude laboral

de control de cumplimiento de los planes de igualdad de las cláusulas sociales algunas están en manos de la administración otras exigen negociación colectiva pero todas merecen el acuerdo con los agentes sociales y solo esa búsqueda de acuerdos para atajar la brecha salarial es un motivo para recomponer la mesa que se disolvió en abril porque en este parlamento nos ha unido reclamar medidas que dignifiquen el empleo y los salarios y que se propicie la negociación colectiva y el lugar para hacerlo es la mesa de diálogo social

abierto ha habido errores y se han asumido el propio lehendakari lo hizo ante este pleno y ahora es el momento de pensar en aquellas personas a las que representamos los partidos políticos los sindicatos y las empresas y quiero hacer aquí

al diálogo a todos ratifico el compromiso socialista de mi grupo y de quienes tienen la responsabilidad de gobernar en propiciar los espacios de encuentro entre los agentes un esfuerzo del que no hemos desistido en ningún momento conscientes de que las formas son tan importantes como el fondo por eso para eliminar suspicacias

vamos a contar con un decreto que consiga una mesa estable

salarios dignos y cotizaciones suficientes para garantizar pensiones dignas desde el sistema público

como refrendamos una amplísima mayoría el pasado uno de marzo es un elemento que nos ha unido a las miles de personas que hemos compartido en las calles el movimiento de nuestros mayores y es un elemento que cuenta desde junio con la oportunidad de corregir el empobrecimiento padecido y al que se condenaba a los pensionistas en el futuro ahora es el momento de dar estabilidad a ese sistema lo tenemos que hacer quienes hemos propiciado el gobierno de pedro sánchez el que va a abrir esa puerta y de forma paralela pensamos en los jóvenes porque nos une ahora una larga demanda socialista

la elaboración de una ley específica que les atienda de forma integral lo mismo que hemos compartido una reflexión y una apuesta que amplía también el calendario legislativo

y también nos une la defensa de otros pilares troncales de la cohesión social como son los que garantizan y el derecho a la educación y en este sentido quiero dar las gracias en nombre del partido socialista a todos los agentes que han hecho posible un acuerdo básico para mejorar la calidad de la enseñanza en nuestros centros públicos reforzar el apoyo

y consolidar el empleo de los docentes hace tres décadas los socialistas sentamos las bases de la escuela pública y la integración de las ikastolas hoy seguimos pensando que el futuro de euskadi se juega en nuestras aulas en los conocimientos y habilidades de nuestros alumnos por eso hay que seguir abonando los espacios de encuentro

la nueva ley y ese pacto contiene los mimbres que veníamos reclamando que los alumnos accedan al inglés castellano y euskera la apuesta por lo público el respaldo a los docentes la innovación las fórmulas para acabar con guetos y segregaciones que solo conducen a perpetuar desigualdades y me refería también a otra pata imprescindible de nuestro modelo social la del derecho a la salud aquí la última gran reforma la emprendimos hace dos legislaturas y estamos en fase

y peleas del pasado reciente biocruces es ya una realidad como apuesta imprescindible por la investigación biosanitaria otra larga muy larga batalla la de contar con un hospital de referencia en eibar para atender las necesidades de noventa mil personas está a punto de ser una realidad como lo son ya

o como se están dando pasos también para la integración de onkologikoa en el sistema público de salud y consolidarlo como punta de lanza en la lucha contra el cáncer

y que han tenido que superar avatares económicos y recelos partidistas hasta que hemos sido capaces de convencer de su necesidad al igual que ha habido que superar recelos hasta conseguir que todos los afectados por la hepatitis cien

los socialistas introdujimos esta demanda en el acuerdo de gobernabilidad y hoy

pero aún en el ámbito sanitario nos faltaba abordar un proceso de estabilización de plantillas y relevo generacional por eso de acuerdo con una parte de los sindicatos se ha impulsado un proceso de oferta de empleo una ope diseñada para dar una oportunidad de calidad

nuestro derecho a la salud y que ha estado empañada por irregularidades los socialistas pedimos desde el principio al departamento máximo rigor y transparencia para investigar qué había pasado

y depurar las responsabilidades que se pudieran derivar esa fase de investigación y reparación está en marcha y nos parece lo más urgente no vamos a jugar con el futuro de noventa y seis mil personas ni con el cuestionamiento de este servicio público

y tampoco vamos a jugar a excusar a nadie esperamos a solucionar lo urgente y que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que no haya la más mínima

sobre esta o cualquier otra convocatoria de empleo público otro derecho que nos acaba uniendo a todos los grupos en una conquista que iniciamos los socialistas en solitario

los socialistas asumimos en el gobierno el despliegue de la ley una tarea complicada pero que ha permitido alinear a las distintas administraciones en el mismo objetivo y hoy

el cuarenta por ciento de la oferta de alquiler es protegido y se está impulsando un ambicioso plan para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y su emancipación el barrio de coronación en vitoria emprende un proyecto de rehabilitación integral en otxarkoaga tienen un plan de renovación tan necesario como demandado por sus vecinos y nos queda recorrido nos queda terminar de convencer a quienes tienen pisos en desuso que les sale más a cuenta ponerlos a disposición de quienes los necesitan nos queda culminar el decreto que consolide el derecho subjetivo pero sin duda el salto que hemos dado en tan pocos años en este derecho nos sitúa a la cabeza de españa y sobre todo

para quienes reclaman de sus representantes políticos que atendamos sus necesidades más perentorias respuestas a quienes más han sufrido la crisis que también nos une a todos los grupos de esta cámara cuando nos hemos ocupado de la margen izquierda de la zona minera de encartaciones

la de recuperar los trabajos iniciados en la pasada ahora con todas las instituciones en línea se deben emprender las actuaciones acordadas

más desfavorecidas como no nos olvidamos de las víctimas del amianto que también nos han unido a todos los grupos en este parlamento pero que habían quedado relegadas al cajón de los vetos del pp

este cambio de gobierno para levantar ese veto que retrasa las respuestas que necesitan como necesitaban el cambio de gobierno en españa los miles de empleados públicos vascos lo necesitaban para eliminar el veto que impedía la recuperación de su nivel adquisitivo

nuestro sistema de protección social un modelo en el que se miran el resto de comunidades porque con todas sus lagunas sabemos que la inversión en la renta de garantía de ingresos ha sido una de las mejores que hemos hecho como sociedad ese modelo requiere una puesta al día

encima de la mesa una propuesta para llegar con más cuantías a más hogares y con mayor empeño donde haya menores y pensionistas para que nadie que lo necesite se quede sin recibirla

y sobre todo para que cada vez lo necesite menos gente porque consigamos

a quienes llevan años atascados en el desempleo porque combatimos la precariedad de los trabajadores que deben completar sus salarios ese es el reto y tenemos un debate pendiente en esta cámara quiero agradecer a eh bildu que el pasado junio pidiera aplazar este trámite en lugar de tirar a la basura la propuesta nunca es buena idea dar

en la cara del gobierno y espero que todos los grupos seamos conscientes de lo que nos traemos entre manos por parte socialista saben

la voluntad sincera de llegar a acuerdos también en esto una voluntad socialista contrastada también para lograr

un sistema público audiovisual en el que todos sin excepción nos sintamos reconocidos una gran mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a los partidos que acaban de propiciar el camino para el fin del sectarismo y de la manipulación en rtve

es de los vascos y debería de ser un acicate para propiciar los consensos en la reforma integral de e i te be como esperamos acuerdos en materia presupuestaria abiertos a todos los grupos sin exclusiones ni vetos tampoco los ha habido en los dos años anteriores y no los habrá en estos y tenemos una buena base un proyecto con objetivos definidos mayores recursos para garantizar los servicios públicos

para afrontar los retos tecnológicos demográficos y ambientales que tenemos tenemos mayores recursos porque se ha acotado el terreno a quienes se escaquean de su responsabilidad gracias al plan de lucha contra el fraude fiscal que impulsamos hace cinco años y porque pagan más quienes tienen más ingresos

en sociedades en las nuevas cuentas queremos incorporar las aportaciones de quienes quieran orientar esos recursos a aquellas cosas que acordamos aquí cada semana

en esa en la que también participamos desde euskadi y es esencial que afiancemos nuestras fortalezas como sociedad la cohesión y la capacidad de transformación de nuestra economía por eso es tan importante que sigamos ganando terreno a la investigación y a la innovación

de ayudar a financiarlas de comprometerlas con el arraigo en esta tierra y para ser más eficaces con las subvenciones por eso es tan importante también que consolidemos como estamos haciendo

como un atractivo con valor añadido con una propuesta que convenza a quienes nos visitan para quedarse más tiempo

que convive con el entorno con quienes residimos en nuestros pueblos y ciudades y con el medio ambiente un sector que ha dado un salto de calidad por una apuesta política inequívoca y porque hemos conseguido borrar la marca de terror que eta imprimió durante medio siglo esa marca hoy ha desaparecido de cara al exterior pero aquí en casa

fernando quirogarena eduardo bergaretxerena

gracias a los funcionarios policiales y a los profesionales de la justicia y el estado de derecho se fortalece cuando reconoce sus fallas y las corrige

que quienes representamos a la ciudadanía seamos rotundos y claros para decir que nadie debió ser amenazado secuestrado torturado ni asesinado

que el daño causado ha sido tan inútil como injusto y que nos comprometemos a construir un futuro en el que asumimos nuestra pluralidad la pluralidad de nuestra sociedad como una de nuestras principales riquezas

los acuerdos históricos son aquellos que suman a diferentes porque todos juntos podamos avanzar en proyectos compartidos en mil novecientos treinta y seis el diputado

para que todos juntos pudiéramos emprender un nuevo camino de concordia y así psoe y pnv sumaron al partido comunista al republicano y anv

unió a vascos de distintos territorios eso es histórico histórico fue el día en el que el lehendakari rubial y el lehendakari garaikoetxea celebraron juntos en la casilla

y junto a ellos la ucd y euskadiko ezkerra histórico fue el día

que instauraba el derecho a la salud que inmediatamente desarrollamos aquí en euskadi con un sistema propio muy innovador

cuando conseguimos que la escuela pública vasca fuera el eje del derecho a la educación cuando aprobamos la ley de la renta de garantía de ingresos o la ley de la vivienda cuando aprobamos la ley de normalización de uso del euskera que ha conseguido que la lengua vasca sea conocida por más gente que nunca

e histórico fue el día en que conseguimos que eta dejara de matar esos son días históricos y en todos ellos hemos estado los socialistas pero no son históricos porque hayamos estado nosotros sino porque nosotros y otros entendíamos qué era lo importante

lo que conquista derechos y libertades en beneficio de todos nacionalistas y no nacionalistas

por eso será histórico el día que consigamos renovar nuestro proyecto de convivencia

vengan de donde vengan y se sientan como se sientan y creemos que es posible hacerlo creemos que es posible ensanchar derechos y ampliar consensos creemos que es posible trasladar un proyecto para el futuro en el que nadie se tenga que sentir excluido

un proyecto viable para que la ciudadanía entienda que este debate que nos ocupa sí era importante

porque realmente les protege sus derechos y abre un nuevo tiempo de convivencia entre los vascos y con el resto de españa dentro de la unión europea

sabemos cuáles son no se ha aprovechado la oportunidad para esforzarnos en encontrar las coincidencias pero llegará el momento de la responsabilidad de cada grupo es nuestra responsabilidad la de quienes ocupamos estos escaños ofrecer una propuesta que ponga a nuestro autogobierno en el siglo veintiuno y que se pueda llevar a la práctica quienes se embarcaron en el proyecto en el treinta y seis acertaron quienes lo hicieron en el setenta y ocho y en el setenta y nueve también

debemos ser capaces de acertar desde luego los socialistas estamos dispuestos a ello tenemos una oportunidad que no queremos desaprovechar porque como he venido relatando en esta intervención es mucho lo que nos une y es ahí donde queremos poner el foco

eta denon erantzukizuna da talde guztiena aukera hori ez galtzea no queremos renunciar a nuestro pasado más reciente que ha hecho de euskadi lo que somos no hemos sido nunca más que ahora así que las miradas al pasado a siglos pasados no pueden estar dominadas por una melancolía injustificada

unir nuestras fuerzas en condiciones mucho peores para sacar adelante el país hoy nos tiene que resultar mucho más fácil el grupo socialista decidió que esta legislatura debía recuperar

la euskadi que reconoce su pluralidad la euskadi orgullosa porque los diferentes nos pongamos de acuerdo

para garantizar los servicios públicos que hacen posibles los derechos de todos y todas capaz de transformarse de prepararse para los retos del futuro una euskadi que quiere acoger

que necesitan que nos coordinemos con eficacia todas las instituciones porque les necesitamos porque la inmigración no es un problema es un reto al que tenemos que dar respuesta

una euskadi que quiere seguir integrada en una europa amenazada por quienes levantan muros de miedos y agravios por quienes se empeñan en nuevas fronteras y que requieren más que nunca de voluntades de progreso conjunto de responsabilidades compartidas

una euskadi en la que como ansiaba el lehendakari rubial todas y todos nos sintamos protegidos pensemos como pensemos y hayamos nacido donde hayamos nacido y esa euskadi necesita que este parlamento sepa darle respuestas y fijarse prioridades

la conquista de la igualdad recuperar un empleo de calidad desde la innovación y la lucha contra el fraude laboral desarrollar los derechos conquistados ayudar en la emancipación de los jóvenes

y la garantía plena de la pluralidad en estas prioridades cabemos todas y todos y mi grupo se compromete en esta tarea también en este curso que hoy empezamos eskerrik asko

para ezker anitza izquierda unida y para el conjunto de nuestra coalición elkarrekin podemos el mayor problema que tenemos en euskadi en estos momentos

que es por cierto en nuestra opinión la verdadera mayoría social del país euskadi está retrocediendo para esa mayoría que sigue viendo como su vida es cada vez más dura

peor pagados con más horas extras con menos derechos y con más peligro para su salud una situación especialmente grave en el caso de las mujeres donde la precariedad y la brecha salarial se han convertido lamentablemente en una marca distintiva de euskadi

de esa mayoría trabajadora llevan empeorando de manera alarmante y sin pausa durante los últimos años sin que este gobierno haya hecho nada por evitarlo alderantziz

del diez por ciento la tasa del paro es una trampa para trabajadoras y trabajadores de este pueblo es una trampa porque solo está siendo posible

unos empleos que no permiten pagar alquiler que no dan oportunidad de emanciparse a la juventud o que no permiten tener una pensión digna señor lehendakari

programas y acciones de gobierno como vacío de soluciones para esa mayoría de currelas y es que hoy usted

a golpe de acuerdos con confebask parece más bien el lehendakari de la patronal pensamos que es inaceptable el desprecio y maltrato de este gobierno a los sindicatos

maltrato que raya lo antidemocrático en ocasiones hasta el punto de que algún sindicato ha denunciado sus políticas ante los tribunales herri honetako langileok

gehiengoa garela aitortzen duen gobernu bat merezi dugu merecemos un gobierno y un lehendakari que tenga como prioridad luchar contra los casi seis millónes de horas extras

en el tajo un gobierno que se ponga del lado de los de abajo y no de los de arriba

a la realidad me remito señor lehendakari nuestra sociedad está fuertemente movilizada en un periodo de supuesta recuperación económica lo que no suele ser normal las mujeres están desbordando las calles los conflictos laborales siguen en aumento y el movimiento de pensionistas

su modelo de epsv privadas que nunca van a estar al alcance de todas que debilitaran el sistema público

un buen negocio para la banca y no es un problema de falta de recursos es un problema de distribución de la riqueza este gobierno ha apostado por un modelo fiscal injusto al servicio de las élites lo pacto con el partido popular un modelo que penaliza las rentas del trabajo frente a las rentas del capital eredu

este gobierno actúa al dictado de los intereses de las élites encarnadas

y pone los recursos del país al servicio de los intereses del capital

por gobierno vasco y confebask a espaldas de las y los trabajadores una demostración en nuestra opinión descarada de cómo hacer políticas al servicio

este gobierno está utilizando nuestra capacidad de autogobierno de la que tanto hablan para poner los recursos del país al servicio de las élites y contra el interés general de la mayoría social mientras tanto su propio partido pretende darnos lecciones de soberanía nacional a diario el debate sobre autogobierno y nuevos estatutos no puede tapar las vergüenzas

porque mañana señor lehendakari podemos ser una comunidad autónoma una nación federada o un estado independiente podemos tener relaciones bilaterales con el estado o multilaterales en un estado federal o confederal republicano para eso se puede contar con nosotros y ya sabe usted cuál es mi opinión

no habrá soberanía popular para este pueblo y para eso desde luego no cuenten con nosotros eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna

de alcaldes ni otro puñado de altos cargos de sanidad todos ellos del partido nacionalista vasco condenados por corrupción tampoco hay otros veintiséis cargos

en araba qué va imaginaciones del personal la verdad es que no deja de ser curioso que este gobierno en su momento de mayor debilidad parlamentaria y política

desde luego es para hacérselo mirar ha visto usted los simpson alguna vez señor lehendakari

le diría que usted vive en la casa de la gominola en la calle de la piruleta

a nadie porque sinceramente no hay forma de entender cómo usted ha podido subirse a esta tribuna y pintar

pero que nadie se equivoque la realidad tampoco es la contraria euskadi no es

la realidad de nuestro país no es ni el país de caramelo del partido nacionalista vasco y partido socialista

medianamente bien no es precisamente por mérito de este gobierno lo es gracias a la gente que trabaja y a la que cuida

a las familias que hacen milagros con el presupuesto familiar a la juventud que innova y emprende

hijas y nietas y a las mujeres que salen a la calle a reivindicar sus derechos pero a pesar de todo este esfuerzo

en euskadi sigue habiendo problemas lehendakariak gaur bere herrialdeko arazoez

oso larriak dira pero le diré más no es que ustedes no sean conscientes de los problemas claro que los conocen

y sabe por qué porque son totalmente conscientes de que son un gobierno sin soluciones

es eso o que quizás el lehendakari tiene un problema grave de memoria quizá sea eso quizás es todo un problema de memoria y simplemente necesitan

pero no se preocupe que aquí está la izquierda vasca aquí está elkarrekin podemos para contarle los problemas reales los cotidianos de la ciudadanía vasca y no solo eso además vamos a poner soluciones encima de la mesa las que le faltan a este gobierno

empecemos por la naval otro año más un año más tarde la naval con problemas y sin soluciones el mayor astillero de euskadi

una de las comarcas más castigadas por el paro que no existe en la euskadi del señor urkullu

o sestao está en marte porque se le ha olvidado

miles de empleos miles está claro que a pnv y pse la angustia de las miles y miles de familias que sufren la amenaza del cierre de su medio de vida

ni se dignan a mencionarlas ya llegan las elecciones y ya irán a hacerse fotos allí a prometer el oro y el moro

nunca cumplen nada de lo que prometen hay que decirlo claramente

no está moviendo ni un dedo por rescatarla espero que no sea

uno de los principales accionistas de la naval pero no nos hagamos mala sangre

un poquito más amable qué le parece que hablemos de las corruptelas del pnv que salpican a este gobierno un temazo horri buruz lehendakariak

estua duela euzko alderdi jeltzalearekin pero la realidad no es la del olvido del lehendakari al contrario es la de la sucesión de sentencias los casos y las comisiones de investigación que le salpican

de forma recurrente el señor erkoreka portavoz del gobierno se esfuerza sin mucho éxito todo hay que decirlo a decir que son casos aislados

y menos aún al partido nacionalista vasco pero claro luego uno ve que veintiséis altos cargos del pnv en araba están imputados por el caso de miguel que en el caso margüello

que en el caso de los purines de karrantza es el alcalde un concejal del pnv

y que además hay otros tantos alcaldes también del pnv casualidad condenados por todo tipo de cosas

ha pasado uno por alto el que aplican a sus amigos de partido imputados y que los va colocando misteriosamente en empresas públicas vascas

a las miles de vascas y vascos que perdieron su tiempo estudiando para unas oposiciones amañadas y repartidas entre amigotes en forma de sobrecitos de verdad

cómplice de este fraude o quizás es que este gobierno

este escándalo debajo de la alfombra la consigna parece que pase rápido

contra esos profesionales ejemplares que han denunciado estas irregularidades más olvidos

pero es que también se le ha olvidado hablar de vivienda claro debe ser que en su euskadi de caramelo

no son estratosféricos e inaccesibles para la mayoría de la juventud de este país pero la realidad es tozuda dos datos el primero ciento treinta y cinco mil personas en euskadi tienen problemas para pagar la hipoteca o el alquiler

estamos cinco puntos por encima de la unión europea en juventud no emancipada de sus familias en su euskadi de caramelo

setenta y uno coma cinco por ciento de la juventud no se ha podido emancipar

esos datos a ese listado tan bueno que nos ha contado esta mañana

aurkeztu dezala porque la juventud vasca no se va la están echando las políticas que no hace su gobierno qué euskadi les ofrece el señor lehendakari una de empleo basura y de alquileres imposibles

señor lehendakari no ha dicho nada de la precariedad laboral habla de bajar el paro pero lo que no cuenta es que lo baja a golpe de empleo basura de contratos temporales y de tiempo parcial hoy en su país de piruleta

tienen una duración de menos de un mes hasta un cuarenta por ciento de ellos son a tiempo parcial un noventa y dos por ciento temporales casi seis millónes de horas extras

para buscar oportunidades y para las personas mayores de cuarenta y cinco años en paro y los de larga duración pero mire hoy

a las veinticinco personas muertas en accidentes de trabajo veinticinco muertes evitables evitables entre otros con mayor control y vigilancia de este gobierno

no merecen ni una sola palabra de este lehendakari la verdad es que viendo la lista de olvidos de hoy del lehendakari a mí me empieza realmente a preocupar su memoria

hablando de los objetivos que cumple se le ha olvidado hablar de uno el compromiso número seis de su plan de gobierno que es promover el diálogo social

el más dudoso honor de haber reventado el diálogo social quizás tenga algo que ver con esa afición de este gobierno

y firmar convenios a traición con la patronal después de bajar los impuestos a la gran patronal

sacarse fotos todas las semanas con ellos y darles un buen pedazo del pastel de la formación profesional

en el nuevo estatuto desde luego acabarán blindando los derechos históricos sí

diálogo y más diálogo es lo que necesita este país y poco diálogo es el que encuentra este país en su gobierno señor lehendakari

entre vascos y vascas para sentar las bases de nuestra convivencia necesitamos diálogo sobre autogobierno necesitamos diálogo en materia de paz y convivencia necesitamos diálogo sobre políticas lingüísticas necesitamos diálogo porque este país nuestra euskadi

fuera a nadie y sobre todo hace falta diálogo porque es posible llegar a acuerdos pero hay que querer esos acuerdos amplios plurales y transversales

en materia de memoria de memoria histórica y de memoria reciente

y no solo a las del gobierno para que la memoria de nadie se quede enterrada en la cuneta para eso también hace falta diálogo

lortzeko asmoa baldin badago es posible un nuevo estatuto avanzado en lo social que nos reconozca como nación inclusivo en lo identitario y que sea legal es posible avanzar en un pacto de claridad

ofrezca cauces democráticos y sin ningún tipo de fractura social para decidir en lo territorial un cauce legal un cauce bilateral y un cauce pactado pero eso una vez más con luz y taquígrafos

abramos dos mesas paralelas no mezclemos los debates una para el estatuto y otra para un pacto de claridad a la canadiense su partido no quiso pero está en su mano rectificar y deshacer el entuerto en el que el señor egibar ha metido en el nuevo estatuto y está a tiempo señor lehendakari déjese

un acuerdo transversal empújelo empezando por su partido por el partido nacionalista vasco y por favor

y no de siglo diecinueve señor lehendakari ha hablado usted de que el estado español debe reconocer su carácter plurinacional cien por ciento de acuerdo sin duda hagámoslo juntos pero oiga a la par ni antes ni después de que usted y su partido se apliquen aquí el cuento y reconozcan también que este país es plural diverso y debe seguir siéndolo

ustedes deberían aplicarse un poquito más en reconocer y asumir la pluralidad de nuestra euskadi y es que si algo ha quedado claro en estos meses es que elkarrekin podemos tenemos un modelo social

y que esa misma izquierda vasca tenemos un proyecto de país en lo territorial e inclusivo democrático

que no tenemos complejos ni prejuicios a la hora de decir no a identitarismos excluyentes maximalismos

y que no tenemos complejos ni prejuicios para decir sí cuando el acuerdo permite un acuerdo amplio plural y transversal

no vamos a dejar de confrontarle en lo social le tengo que seguir señalando aquella lista de olvidos con la que he empezado en educación

de la segregación escolar se ha olvidado de la situación de la educación pública nuestra igualdad de oportunidades como sociedad se va por el sumidero de la segregación escolar

miran hacia otro lado urkullu jauna

berarekin eta zutik eusten dion komunitatearekin le decía que va a ser mucho

para tantos olvidos no sé si osakidetza tiene presupuesto para tanto pero como quizás

de la privatización o de lo privado para ustedes no es un problema privatizar eso sí que no se les olvida nunca lo tienen muy bien aprendido su gobierno es el campeón de externalizar y de privatizar que se lo digan a osakidetza nuestro servicio público de salud

el modelo mixto público privado sería interesante escucharle hablar algo de la reciente sentencia del tribunal superior de justicia que les acaba de dar un sopapo al rechazar sus externalizaciones

tener fin también hay otro olvido las políticas de igualdad modélicas

también ha venido hoy usted sacando pecho de la iniciativa de la brecha salarial y aquí sí que le voy a recordar tres cosas la primera

elkarrekin podemos no de su gobierno la segunda

que lleva reunirse casi cuatro meses y se creó en marzo la tercera que sinceramente no sé de qué chistera se han sacado ustedes el conejo de que la estrategia que van a presentar es fruto de un proceso participativo señor lehendakari mire

pero es que lo suyo de esta mañana no ha tenido nombre se ha olvidado de nuestros pensionistas de nuestras personas mayores

aunque es cierto que le han dado más de un disgusto con sus movilizaciones permanentes en la calle el problema es evidente el sistema de pensiones tiene dificultades

qué soluciones propone va a hacer como el señor rementeria y va a recomendarles una epsv y unos planes privados de pensiones

para nuestras personas mayores la realidad es que esa es su alternativa para los servicios públicos la privatización lo que ustedes llaman sistemas concertados

del lehendakari por su falta de diálogo en todas estas cuestiones se ha escuchado muy bajito demasiado bajito parecía más una cuartada para que no le digamos nada que una solución sincera de su responsabilidad en todos estos fracasos

con la rgi lo que hacen es recortar y recortar y recortar

es esa prestación completamente criminalizada que dio pie que la señora artolazabal

deben ser cosas de este país de piruleta en el que vive este gobierno en el que la vivienda la cesta de la compra y la factura de la luz se pagan

cómo con seiscientos euros alguien puede pagar un alquiler medio de novecientos ochenta euros una factura de la luz de sesenta y cinco euros y una cesta de compra de cuatrocientos cinco euros

por qué siempre que su gobierno y usted hablan de personas migrantes insisten tanto en que están de paso pero oiga nunca dicen que euskadi también

una tierra de acogida digna y qué curioso y selectivo a este olvido señor urkullu

cuando sus alcaldes los que son de su partido como el señor aburtu pusieron verjas en frontones para impedir

y de la guerra y que su gobierno está siendo incapaz de atender correctamente a golpe de improvisación y de titulares vacíos este domingo este domingo

ciento treinta personas desayunaban en la calle atendidas por una ciudadanía solidaria esa es la verdadera cara de la acogida del pnv y de su gobierno voy terminando amaitzeko urkullu jauna

y viene en plan soberbio a decirnos que ha completado el setenta y cinco por ciento de su plan de gobierno

sinceramente creo que no solo se ha equivocado de día para contarnos esto es que se ha equivocado de país

y de gominola el que vive la ciudadanía vasca es un o muy diferente

de miseria en el que uno un alquiler es de lujo en el que la vuelta al colegio deja los bolsillos de la familia limpios en el que la igualdad de las mujeres es un reto

con la mínima hacen malabarismos para llegar a fin de mes en el que la educación la sanidad y tantos otros servicios públicos

sinceramente espero que no encuentre en esta cámara

porque sería verdaderamente malo para euskadi para la ciudadanía y para la izquierda si es que quien se traga este sapo

usted y su gobierno quieren buscar apoyo en elkarrekin podemos en la izquierda vasca nuestra puerta está abierta

en su acción de gobierno que hoy visto lo visto no les veo muy dispuestos a emprender eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

pues en primer lugar porque algunos se conforman con decir que estamos a la cabeza de españa

es que estamos a la cola de europa lo grave es que la vasca es la comunidad del estado que mayor poder adquisitivo ha perdido es decir que los de abajo cada vez nos pisan más los talones y lo de arriba los países europeos de referencia cada vez

porque aquí sí existe una correlación de fuerzas a diferencia de españa para llevar a cabo estas políticas hori bat

lidergoa falta izan zaizuela gobernatzen duen gobernua falta izan dela a veces pienso que los datos económicos serian similares incluso si no hubiera

de la situación porque un gobierno tiene la obligación de proteger

de prevenir para cuando acechen las dificultades de aprender de los errores del pasado y tiene la obligación de remover obstáculos

solventes tiene la obligación de cuestionar y corregir sus políticas si es necesario no basta con aprovechar el viento de cola hay que marcar el rumbo

no es suficiente gestionar hay que liderar una gran parte de las inversiones sociales a las que se ha hecho referencia aquí hoy son pura inercia

y en las que este gobierno no ha mostrado capacidad de corrección y hace falta determinación para todo eso

eta oso argi geratzen da datu horrekin eta etorkizunean izan beharko genukeen konfiantza galtzen ari gara y no podemos permitirnos vivir en una sociedad con miedo al futuro

a tener nuestro propio proyecto de vida a aspirar a mejores cuotas de bienestar

instalarnos en la resignación en el conformismo que denota la descripción que esta mañana ha hecho el lehendakari necesitamos certezas y no solo ayudas necesitamos políticas públicas bien diseñadas que garanticen digna diseñadas para tiempos de bonanza pero también para cuando la situación se complica para afrontar retos tan acuciantes como el demográfico que no por mucho hablar se va a solucionar las políticas públicas deben garantizar la igualdad de oportunidades para evitar cualquier discriminación por ser joven o por ser algo mayor o por ser mujer o por la procedencia de las personas pero también para evitar cualquier sospecha de favoritismo de corrupción y de enchufismo

de la sociedad que tenemos no podemos permitirnos que una sociedad como la vasca piense o en una sociedad como la vasca

la sombra que te cobija es mejor o es peor y por desgracia que piensa eso y es que están aflorando cosas

casos en los que están implicados altos cargos de la administración con comportamientos vamos a decir ni ejemplares ni éticos como tampoco es ejemplar el proceso que se ha llevado a cabo en la oferta de empleo público de osakidetza la gestión ha sido nefasta

sus responsabilidades políticas al respecto repito va a tener que asumir sus responsabilidades políticas al respecto porque si no lo hacen ustedes nosotras les obligaremos a ello

existen sospechas de amaños de tejemanejes por parte de altos cargos de la administración

para garantizar la transparencia la legitimidad de nuestras instituciones políticas creemos que es necesario un proceso de regeneración democrática no vamos a consentir

ni mucho menos la humillación y vuelvo a repetir la humillación de las mujeres como el que se vivió hace quince días en hondarribia herritarrak ez daude

horregatik garrantzitsua da kalea ezagutzea conocer la realidad a pie de calle

los grupos de presión o los informes de consultorías que esconden intereses que no concuerdan con los de la ciudadanía ez dago ez dago herritarrik gabeko

trabajamos para conseguir un país que sepa afrontar el reto de la transición ecológica no queremos hablar de incineradoras ni de trenes que no van a ninguna parte trabajamos para tener un país con un modelo productivo basado en una industria avanzada fundamentada

un país que genere y reparta la riqueza de forma justa y sostenible que garantice viviendas empleos

y para todas un país con un sistema educativo que conforme una sociedad culta crítica y capacitada para afrontar

del siglo veintiuno una ciudadanía donde las mujeres nos sintamos libres y emancipadas un sistema educativo

un país que no deja a nadie atrás que conciba la inclusión como un derecho inalienable articulado en torno al sistema de servicios sociales público con un sistema de protección colectiva que nos permita mirarnos al espejo como sociedad y ver el reflejo de una colectividad

queremos políticas públicas para el buen vivir buscamos un sistema de servicios y derechos sociales de vanguardia financiado por una política fiscal progresiva que permita a las personas elegir

y de vida un país que cuide de sus jóvenes les forme y les dé oportunidades para la emancipación

para decidir su presente y su futuro que tenga los instrumentos para poder desarrollar las políticas que determine democráticamente sin que desde fuera

las cosas en la responsabilidad de ofrecer a este pueblo un futuro de esperanza es necesario es

todos los instrumentos necesarios y que tengamos voz propia en el mundo

agendas políticas a agendas sociales porque lo social es político diré más no hay nada más político que lo social

darle la vuelta a la miseria o a la esclavitud laboral garantizar salarios y pensiones dignas

lo que hay que cambiar es el modelo de relación con el estado y en este panorama en este parlamento hemos constatado que se puede progresar de forma notable que se puede progresar de forma notable cuando existe voluntad política para ello hemos acordado las bases para la reforma del autogobierno que recogen los derechos imprescindibles

pueda afrontar el futuro con esperanza akordio bat dago

defendatu eta gauzatu ahal izango dugulako gure proiektu politikoa es un buen acuerdo porque conecta con la voluntad mayoritaria de este pueblo queremos decidir aquí

los derechos civiles políticos los derechos nacionales los derechos sociales están intrínsecamente unidos no se pueden trocear no se pueden desligar por eso aparecen juntos

aquí con nuestras normas no tener seguridad social significa no poder decidir sobre nuestras contingencias en materia económica el control de nuestros activos públicos significa no tener capacidad de incidir en un tercio de nuestras finanzas de nuestra riqueza significa no poder decidir sobre alrededor de ocho mil millónes de euros lo que no vale es

y luego decir que no los podemos garantizar porque españa o porque madrid no nos deja eso es hacerse trampas al solitario

impone quien la niega no impone quien opta por respetar la voluntad de la gente impone

expresarse lo contrario reprimir y utilizar la fuerza contra peticiones razonables

supone un claro abuso de poder incompatible con una democracia en el siglo veintiuno gehiengoak onartutako akordioa daukagu

zer esan nahi duzun qué quiere decir cuando habla de garantizar el recorrido institucional de este acuerdo mayoritario por qué cree que este acuerdo mayoritario no lo puede tener

que pueda tener recorrido institucional más allá de la voluntad política demokrazia eta askatasuna helburu orain arte egin duen bezala elkarrizketa eta

con la firme voluntad de llegar a los mejores acuerdos posibles pero teniendo muy claro el noble significado de ambos conceptos que no se pueden confundir ni con la subordinación ni con la sumisión ni mucho menos con convertir a una de las partes en la recadista de la otra giza eskubideez hizketan hasi naiz eta

egon behar dute legea bete egin behar da eta dispertsioarekin amaitu egin behar da por lo tanto señores del partido socialista obrero español y señores del partido socialista de euskadi

herritarren interesak benetan serio hartzera porque la maraña de datos económicos indicadores tasas no pueden esconder la realidad

hombres y mujeres de este país sus sueños y sus necesidades y sus anhelos y sus dificultades

que se siente estafada por las instituciones que está a punto

como nos advierten los estudios sociológicos aunque la verdad creo que afortunadamente vivimos en un país con un fuerte movimiento social con un fuerte movimiento sindical con un fuerte movimiento vecinal

pero este gobierno que está en minoría no tiene en este momento ni ambición ni determinación

ha puesto encima de la mesa y es importante tomarse en serio la ciudadanía porque fomentar la resignación solo conduce al auge

en buena parte de europa por eso les quiero pedir que pongamos los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otro

ante todo creemos que son momentos cruciales en los que se debe actuar con altura de miras y con liderazgo aukera daukagu iraganeko

neurrian baina hor jaurlaritzak egiten duena da lo de la escala humana es que es así si el eje de tu actuación política es la persona

para intentar socorrer en un caso ayudar proteger para poder incentivar motivar cualificar

y claro el lehendakari hace en nombre del gobierno un repaso de todo eso señores quedan dos años hemos centrado

participada por algunos en parte puntualmente en la medida en que hay coincidencias aquí en el parlamento pero quedan dos años decisivos esaten du bere legealdirako

tranquilo que si por alguna circunstancia el partido socialista se solivianta por el tema del derecho a decidir ya estaremos nosotros para darle cobertura ese papel supervisor pasados supervisores de la política vasca este pueblo ha tenido muchos y afortunadamente casi todos han desaparecido

de qué estamos hablando y se dice en las famosas bases tan comentadas y denostadas por algunos

reafirmar y completar el estatuto actual se está hablando de recuperar lo mutilado o lo menguado y ampliar

competencial y decía en euskera

ni aquí con la mayoría que obtuvo en aquel momento

seguramente no saldría y por eso estamos diciendo que además de recuperar y completar hay que ampliar el quantum y sobre todo hay que cambiar el modelo de relación

radicalmente democrático políticamente comprometido innecesariamente ilegal pero

incumplido en muchas de sus facetas sociales sobre todo en las referidas al régimen económico de la seguridad social que es tanto antes se ha cifrado aquí en ocho mil millónes

de la comunidad yo digo que salvo aplicaciones antidemocráticas salvo que se pueda

instalar nuevamente el ciento cincuenta y cinco también para la comunidad política vasca

penal yo creo que lo que libre democráticamente y mayoritariamente este parlamento

atendido y respetado y negociado por los poderes del estado porque hoy por hoy con la legislación vigente necesita de una ley orgánica bueno eso tiene que ser así baina

pero antes me refería a lo que cambian los tiempos y alguien dirá bueno pues ya vuelve a sacar algún papel pero

la asamblea de parlamentarios vascos diputados y senadores cuando preparan el proyecto de estatuto y entre otros estaban marcelino oreja txus viana

pero también aparecen aquí enrique múgica nicolás redondo ramón rubial y josé maría benegas dice el artículo uno y después lo comparáis con las bases a ver dónde está estriba la diferencia

como expresión de su realidad nacional y para acceder a su autogobierno

por no hablar del artículo dieciocho referido a la seguridad social

del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le puedan corresponder

esto no aparece ha desaparecido del texto actual pero esta era la propuesta original pensamiento compartido

dónde se ubican las actuales bases cuando son coincidentes

hasta en la letra de lo que se estableció en el proyecto de estatuto

porque antes he hablado del diputado prieto y del diputado aguirre como ustedes conocen lo que ha sido

de junio de este mismo año la actualización de los derechos históricos de aragón que elkarrekin podemos ha votado a favor no sé si esto es

historicista identitario o qué

es que aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral cuya identidad jurídica

así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento

el carácter originario y la imprescriptibilidad esaten du

son anteriores a la constitución española y al estatuto de autonomía

al no emanar de ellos han de ser respetados por las reformas que puedan afectar a esas normas los derechos históricos no prescriben por falta de uso ejercicio o reclamación hasta ahí la cita eskubide historikoak anakronikoak

en cortes con el diputado prieto quiso introducir

entonces al artículo primero del estatuto del treinta y seis que se aprobó el uno de octubre del treinta y seis en plena guerra esta enmienda este voto particular lo presenta el cuatro de julio

con otro diputado carlos echeguren y dice que se añada al primer artículo que el régimen que aquí se establece no implica prescripción extintiva de los derechos históricos de álava gipuzkoa y bizkaia

cuando las circunstancias lo deparen estriba en la restauración foral integra de su régimen político administrativo evidentemente no salió porque entre otros el diputado prieto votó en contra en nombre de la republica pero también

y pretendía otra cosa a parte de la introducción de este párrafo que apareciera una referencia a la derogación de las leyes abolitorias que entonces no se consiguió y en el setenta y ocho sí que la derogatoria dos

uztailean sinatutako artikulu batean en relación a las bases y principios

y en referencia a eh bildu dice hacen política porque la democracia admite la pluralidad con la palabra y sin pistolas

y así ha sido y así es pero me pregunto si podríamos seguir sosteniendo ese relato si el nuevo estatuto cristaliza el proyecto político de quienes mataron por la autodeterminación en realidad es una pregunta que traslado al pnv hori

sabe que las bases y principios que se han aprobado tienen un fundamento inequívocamente democrático y él

las bases aprobadas con la violencia de eta lo voy a dejar en que es una absoluta irresponsabilidad una absoluta irresponsabilidad que no sé a qué obedece el que un dirigente socialista que ha sido vicelehendakari

deliberadamente mezcle lo aprobado por esta cámara

con la violencia de eta lo dejo ahí baina aniztasuna azaltzea momentu honetan aniztasun falta

eta hori ukatu nahi zaio herri honi nonbait pero la pregunta es otra porque hoy también he escuchado otra reflexión y creo que era de sí idoia mendia cuando decía entre el todo o el nada yo cuando aparece lo del todo o nada no sé qué se quiere pero cuando hemos formulados

hemos discutido sobre qué ámbito competencial en su caso los blindajes y demás yo me pregunto en términos de crecimiento económico de

o incluso de justicia social en qué perjudica

o qué no gusta para la ciudadanía vasca el que las instituciones vascas pudieran tener competencias plenas en materia sociolaboral

en qué le perjudica a la ciudadanía vasca eso es el todo o la nada es que tenemos que admitir el cedazo de ceoe y ugt y comisiones y esta pregunta también va a podemos

o en sistemas de protección o en políticas pasivas o sistema de pensiones

materias o competencias también en cuestiones de migración en qué perjudica a la ciudadanía vasca no no digo en qué perjudica no no menos aspavientos no en qué perjudica y sí

en materia educativa o sanitaria en qué perjudicaría a la ciudadanía vasca

el que fuera concebida y reconocida como una policía integral con derecho propio

o el concierto económico que pudiera también tener esas posibilidades de adecuación y adaptación no cuando al estado

en qué perjudica en qué perjudica el que las instituciones vascas puedan defender directamente las competencias en las instituciones europeas

el que pudiéramos podamos tener selecciones deportivas en todas las disciplinas que así se decida con

digo en qué perjudica a la ciudadanía vasca la respuesta está clara en nada en nada no le perjudica en nada nada entonces por qué se está vendiendo la otra versión

en nada por qué porque no se nos quiere permitir

de nuestro propio futuro con los instrumentos necesarios para afrontarlo abordarlo y a quién molesta a quien tiene una concepción unitaria de su estado de su estado que no admiten una realidad diferente a la suya y esa es la cuestión de fondo de la territorialidad del conflicto con cataluña etcétera etcétera

que tiene una identidad prevalente que obliga

a todo el mundo a que su suerte como futuro colectivo

pase por el cedazo de sus decisiones lo único que está creando son focos de conflicto

aipamen orokorrak komentatuko ditut el señor alonso ha empezado por decir que estamos ante un cambio radical a peor

ha sucedido con la moción de censura oculta el señor alonso por cierto lo que él bien sabe

la realidad de las consecuencias de la sentencia del caso gürtel en la que se alude directamente al propio partido popular lo oculta señor alonso y sabe que la causa de esta situación además no es por la actitud del partido nacionalista vasco

que era su soporte lo sabe señor alonso en todo caso ha acusado a este gobierno de exigir de

o querer pasar primero o rápidamente la factura al gobierno español ha planteado un capítulo de falsedades con una identificación del estatuto de autonomía ha hecho referencia a europa y al documento de visión de europa o de la europa del futuro sobre el futuro de europa

hemos planteado y solamente ha hecho referencia a una parte de ese documento a una parte de las siete que contiene el documento de la visión sobre el futuro de europa ha hecho referencia también a los años mil ochocientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y seis con las leyes abolitorias

interpretado usted en relación a que como si yo hubiera dicho algo euskadi es un país idílico con unos derechos históricos oiga ya le ha contestado el señor egibar y no voy a profundizar ni siquiera en la mención al artículo uno y al artículo dos

en su caso a lo que es la disposición adicional única del estatuto de autonomía a la que he hecho referencia también en la intervención de esta mañana como también de la disposición derogatoria de la propia constitución española y la disposición adicional primera de la constitución española en cualquier caso

y ha planteado un concepto de nación que nos imputa o me imputa también vinculándolo como que si yo esta mañana hubiera planteado un órdago

que he exigido o que he planteado ha hecho referencia a la pregunta con la que yo esta mañana también emplazaba retóricamente aquí en el parlamento vasco qué otra alternativa nos queda

dos noes que recibimos permanentemente bien

entre el gobierno vasco con el partido popular o no se sí con el partido nacionalista vasco y el partido popular dura una semana no voy a entrar en esa cuestión a los hechos me remito entrando en el apartado de repaso balance el calendario legislativo las reformas la educación pisa evaluación diagnóstica el modelo cautivo

ha hecho referencia a los jóvenes lanbide la precariedad la temporalidad el emprendizaje como intervencionista central ha hecho también una auto identificación en la necesidad de una política liberal

no cumplidos al sistema social con la no recuperación la reforma de la renta de garantía de ingresos

ha obviado usted también esa petición del partido popular ha hecho referencia también a la caída del empleo en agosto

a la medida a conveniencia del gobierno vasco ha entrado por último en el apartado de eta y la vinculación con el derecho de autodeterminación y me pide o me exige que dé un paso atrás que rectifique que estoy desperdiciando las oportunidades

y también ha hecho una referencia a la labor de notario y en relación a la comisión técnica o la comisión jurídica de expertos

el tono amenazante que yo haya podido proferir en la sesión de esta mañana diciendo por último que las palabras en mi caso las lleva el viento partido socialista la secretaria general

ha planteado el espíritu con el que el partido socialista se conduce en la cultura del acuerdo entre diferentes y comprometido con explorar las coincidencias y en administrar también las diferencias y no cejar en la búsqueda de acuerdos

y no acuerdo entre los partidos políticos que participan de la ponencia de autogobierno la modificación de la constitución en base a lo que se ha podido interpretar también de lo que yo haya dicho esta mañana en cuanto a la confederabilidad o al federalismo

y las acciones del gobierno vasco según el programa de gobierno que la propia portavoz del grupo socialista ha reconocido también

históricos en base a la concordia y cuáles han podido ser los días

también en nuestra sociedad oportunidades a aprovechar en el curso que comienza con un proyecto integrador inclusivo y efectivo y es mucho

la referencia que yo he extraído de la intervención de la señora mendia

una referencia al mayor problema que es la precarización

con la precariedad y la brecha salarial las mujeres que son las que más lo soportan y ha identificado como esta es la seña de identidad de euskadi

he expuesto esta mañana la calificación siempre del lehendakari y la patronal el mal trato a los sindicatos la movilización de la sociedad el modelo fiscal injusto las referencias a las epsv también en beneficio de la banca ha dicho

suscrito con confebask al servicio de los poderes de las élites contra el interés de la mayoría social y que si se habla de soberanías por último también ha de estar al servicio de la soberanía popular en el caso del señor martínez la arcadia una euskadi de caramelo de piruleta de gominolas pero no niega también lo contrario que puede haber avances también

ha insistido en la arrogancia que parece que muestro o que mostramos y la incapacidad para afrontar los problemas y que queremos olvidarlos y ha hecho un listado de los problemas que parece que queremos obviar o que quiero olvidarlos nos ha calificado también de publirreportaje de los problemas de memoria que yo pueda tener personalmente las soluciones a la larga lista de olvidos y algún tímido susurro que he

expresión ha hecho una mención a la naval ha entrado después obviamente en las corruptelas que salpican a este gobierno

conozco las dos proposiciones no de ley que han presentado también ustedes con elkarrekin podemos

ha hecho referencia a la emancipación de la juventud a los alquileres a la precariedad laboral a la siniestralidad laboral al diálogo social al diálogo en muchos ámbitos posteriormente

y a lo que pueda ser la posición ante lo que es la iniciativa legislativa popular osakidetza una acusación de privatizar

con lo que es el concepto de la externalización nuevamente la mención a la brecha salarial a la privatización también de las pensiones la igualdad

ponerme la nota ya definitivamente un suspenso en diálogo y también acusarme de los recortes en la renta de garantía de ingresos en lo que también es una política no clara en lo que es migración y por último me ha denunciado la falta de humildad

eta esan egin duzu a la cabeza de españa y a la cola de europa gero sartuko naiz eta gero

y el grado de cumplimiento del programa hemos trabajado para alcanzar acuerdos y consensuar las políticas públicas y sin duda tenemos un elemento clave como son los presupuestos

del gobierno es la misma que hace un año y mi actitud la misma que hace cinco años hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos en las prioridades de euskadi y podremos hacerlo de nuevo porque nuestra actitud no ha cambiado nuestra prioridad es afrontar este momento trascendental garantizar las políticas sociales

cada año hemos destinado más recursos a las políticas sociales y también lo haremos el próximo he comprometido y así lo he anunciado esta mañana que por primera vez destinaremos más de siete mil millónes de euros a gasto social más de siete mil millónes

a todo el presupuesto del gobierno vasco en el año dos mil cinco hace trece años

todo el presupuesto del gobierno vasco y el año que viene siete mil millónes a gasto social

fortalecer el crecimiento económico la inversión propia crecerá

que en los últimos cinco años son dos compromisos concretos que pueden facilitar el acuerdo para los próximos presupuestos y tenemos que ser capaces de elevarnos y alejarnos del ambiente de confrontación política que se vive en el estado que se ha querido reflejar en la sesión de esta tarde de ese clima preelectoral permanente tenemos que ser capaces de elevarnos aprobar los presupuestos invertir en estabilidad euskadi en dos mil diecinueve va a seguir creciendo esa es la garantía que quiero trasladar a la sociedad vasca hay proyectos hay recursos y no dudo que puede haber acuerdos las puertas siguen

y dicho esto como preámbulo también y como declaración de intenciones vuelvo también otra vez a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios y lo que sí me ha parecido una vez hecha la constatación de las críticas que acepto asumo por parte de los portavoces parlamentarios en algunos casos estoy dispuesto a debatirlas en otras cuestiones en nada estaré de acuerdo obviamente para mí la intervención señor alonso suya como portavoz del grupo popular vasco ha sido una intervención

según usted el estatuto no está cumplido el pueblo vasco no existe y los derechos históricos no fueron abolidos

el estatuto no está cumplido por culpa de la parte vasca

aprueba por una mayoría total y digo total no mayoría absoluta y digo mayoría absoluta podría decir por lo que este parlamento ha acordado este mismo año con el voto en contra de ustedes como grupo popular vasco

porque no es la primera vez que el parlamento vasco aprueba también una proposición no de ley instando también al gobierno español con sus votos con los votos del partido popular recordemos también los plenos de los años noventa y uno noventa y tres también en lo que era la relación

y yo le hablo de un país vasco creciente y que quiere seguir creciendo y nunca en contra de nadie señor alonso

cuál es su política y otra pregunta más qué ha cambiado del año pasado a este sí sí no dirija usted la pregunta al partido nacionalista vasco o al gobierno vasco qué ha cambiado

qué ha cambiado aquí porque nosotros hemos cumplido todos nuestros compromisos y la puerta

señora mendia y al grupo socialista agradezco el tono y comparto las preocupaciones y retos que ha planteado empleo

brecha salarial lucha contra la violencia de género o garantizar nuestro sistema de protección social están recogidos en nuestro programa y nuestro compromiso se mantiene la experiencia de colaboración y de trabajo conjunto entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi en un gobierno de coalición como el que presido

y siguiendo esta buena práctica en materia de autogobierno el esfuerzo para ensanchar el acuerdo debe ser bilateral y este es mi emplazamiento también en las instituciones vascas a los partidos políticos vascos y también a los poderes del estado español elkarrekin podemosi

señor martínez por mi memoria no se preocupe por mi memoria sino por la visión distorsionada de la realidad que usted ha presentado

no quiero hacer ningún chiste porque para hacer chistes hay que saber hacerlos eso mismo le digo a usted

este país es más serio de lo que usted cree este país es más serio de lo que usted cree señor martínez

avanzar y descalificar sin rigor desde esta tribuna parece gratis

gratis pero no es honesto hacerlo de esa manera no es honesto ha caído usted en el maniqueísmo

y lo que va bien es gracias a los demás ha venido a decir que aquí está elkarrekin podemos para sacar el país adelante me habla usted de falta de humildad no le voy a decir que le sobra soberbia y le falta sentido de la realidad le falta verdad señor martínez le falta verdad euskal herria bilduri

euskadi es una sociedad viva y dinámica sí es una sociedad viva y dinámica de la que podemos sentirnos orgullosos y yo me siento especialmente orgulloso hablo de la sociedad y esta sociedad en muchos aspectos es

formación profesional dual industria cuatro punto cero sanidad equilibrio social

que seguir remando y creciendo porque tenemos muchos retos y soy el primero en decir que necesitamos la colaboración de todos y de todas eso es

creo necesario insistir en la recuperación económica y en que la recuperación económica es un hecho pero no es suficiente que estamos saliendo de la crisis yo no he dicho que hayamos salido de la crisis

que hayamos salido de la crisis alguien ha dicho que se dice que hemos salido de la crisis se dice es impersonal yo hayamos salido de la crisis estamos saliendo de la crisis gracias al esfuerzo colectivo y nos corresponde asentar las bases de los sectores económicos de futuro industria cuatro punto cero digitalización de la economía innovación se ha dicho que tenemos problemas ahora bien recordemos que hasta el primer trimestre del año dos mil trece hace ahora cinco años y medio hasta el primer trimestre del año dos mil trece euskadi estaba en recesión y que llevamos veintiuno trimestres consecutivos de crecimiento veintiuno trimestres consecutivos de crecimiento

que desde entonces se crea empleo y que en los últimos doce meses el paro se ha reducido

que mantener esa tendencia y yo siempre hablo de tendencias y por mucho que cada fin de mes aparezca unos datos que se da a conocer al primero

con respecto al mes anterior y que los datos sean positivos o negativos nunca me paro en los datos de ese mes anterior sino en la tendencia en la tendencia

y creo que en los últimos doce meses como digo

y mejorar la calidad del empleo y esta mañana he aludido a la mejora de la calidad del empleo es la prioridad del gobierno y en esa línea avanzan nuestras líneas nuestras nuevas o nuestras políticas oportunidades de empleo para

o planes especiales de formación y empleabilidad aipamen orokorrak egingo ditut zuek

ez nago konforme la primera critica genérica que se hace es la que se refiere a la autocomplacencia o bien por falta de autocrítica o que no refleja el país real

de mí que la autocomplacencia las y los consejeros del gobierno

y que queda mucho camino por recorrer tenemos por delante el reto de aumentar el empleo y reducir la precariedad laboral especialmente entre la juventud

pública y privada el reto de avanzar en la igualdad y reducir la brecha salarial

el reto de la convivencia y la defensa de los derechos humanos el reto de la natalidad el reto de la internacionalización el reto de garantizar la sostenibilidad de las políticas sociales tenemos un programa de gobierno y unos compromisos con la sociedad que vamos a cumplir y estamos a mitad de legislatura nada de autocomplacencia por lo tanto hoy he citado sesenta medidas e iniciativas concretamos que vamos a poner en marcha

y tenemos que seguir remando la segunda crítica se refiere al empleo la precariedad laboral los salarios se ha planteado la inacción del gobierno como que simplemente pudiéramos estar a la espera con unos datos de paro muy negativos con unos contratos de miseria la mayor temporalidad

hori delako gizartearen aurrean hartutako konpromisoa y los resultados de ejecución del programa marco son positivos se ha incrementado señor alonso se ha incentivado la creación de quince mil ochocientos empleos en el dos mil diecisiete lo cual supone un dos coma uno por ciento este año se estima que se crearán

lo cual supone un uno coma nueve por ciento y estamos en la previsión de los trece mil doscientos el año que viene estamos por lo tanto en la buena dirección

evolución en la afiliación a la seguridad social en euskadi a la que usted ha hecho referencia

las afiliadas a la seguridad social en el año dos mil quince

en el año dos mil diecisiete el año pasado novecientos veintinueve mil personas y hoy este año son

las afiliadas a la seguridad social señor alonso es cierto que agosto es especialmente negativo porque vencen los contratos de la temporada turística y aun así señor alonso también se lo recuerdo en agosto este agosto hay

que en agosto del año pasado y las personas registradas en lanbide son

hay que seguir mejorando pero insisto estos son los datos reales y el paro bajará sí del diez por ciento el próximo año

usted referencia a los impuestos especiales mire si no se hubieran concertado los impuestos especiales estaríamos pagando un cupo inferior puesto que del

el seis coma veinticuatro de los ingresos no concertados y me pregunto se concertaron el año mil novecientos noventa y siete con un gobierno del partido popular

recaudamos los impuestos especiales pero están ajustados están ajustados y pagamos al estado cerca

es un objetivo prioritario del gobierno y del conjunto de la sociedad es evidente que tenemos que mejorar

el número de contratos indefinidos firmados ha crecido un cincuenta por ciento desde el año dos mil nueve hasta el año dos mil diecisiete entre enero y marzo se han firmado veintiuno mil contratos fijos un once por ciento más que en el año dos mil diecisiete

a los salarios y reconozco que los salarios han sido la parte más débil de la crisis es preciso que los salarios sigan recuperando poder adquisitivo ahora bien
los salarios vascos se encuentran a la cabeza y crecen isiltasuna mesedez eskerrik asko

los salarios vascos se encuentran a la cabeza y crecen en mayor medida que en el estado los convenios más recientes consolidan subidas por encima del dos por ciento

y las empresas más competitivas son las que pueden ofrecer mejor salario se ha hecho referencia al diálogo social reconozco las dificultades

ela y lab dijeron que no creen en la mesa del diálogo social

es necesaria y beneficiosa para todas las partes nos comprometimos a presentar una propuesta de normativa que regule los objetivos

y lo hemos hecho lo hemos hecho y estamos en la fase de negociación con los interlocutores sociales y empresariales

hemos recibido las alegaciones que los agentes

nos han hecho llegar y dando respuesta al mandato de este parlamento

de este parlamento y el mandato de este parlamento no es solo la proposición no de ley que se aprueba sino también las proposiciones no de ley que se presentan y se rechazan el mandato de este parlamento hemos el acuerdo marco para crear cien mil empleos en los próximos años

lo hemos remitido mire creo que todas y todos nosotros tendremos eso como bagaje propio personal yo como lehendakari

de que las más de las veces se hacen entrevistas públicas con el ánimo

bueno el titular lo ha puesto el periodista o la periodista no quise decir eso

de lo que es también el juego también ante la opinión pública de querer elevar el listón

referida al acuerdo marco con confebask y las posiciones que se hayan podido verter en esta misma semana una semana que concluye con un esfuerzo

en la gestión de ese acuerdo marco de confebask olvidándose como se está olvidando el objetivo fundamental que es la

y este es el grave problema que tenemos que olvidamos cuál es el objetivo del acuerdo marco el objetivo del punto uno de ese acuerdo marco cómo dar respuesta a la necesidad que pueda existir de cien mil puestos de trabajo según la encuesta

por encargo de confebask bien pues desde el primer minuto que yo vine aquí y reconocí el error

desde el minuto uno nos hemos puesto manos a la obra para intentar allanar el camino de lo que es

que conduzca después a la mesa de diálogo social en fase de regulación

ni los contenidos de lo que entre los diversos agentes hemos hablado pero desde luego la voluntad de este gobierno y del lehendakari es porque la posición del gobierno es una y es consensuada y es compartida y nuestra voluntad es facilitar ese diálogo social para lograr más

es cierto que el índice de accidentabilidad se ha incrementado este año en un cero coma uno por ciento respecto al año anterior y es una mala noticia

atajar la siniestralidad todo accidente grave y mortal se investiga a fondo por parte de osalan y la inspección de trabajo somos

ante los accidentes y este gobierno seguirá trabajando con las empresas y con las personas trabajadoras para incrementar la seguridad en el trabajo

de todas y de todos la tercera crítica es la falta de compromiso con las políticas sociales se ha planteado la necesidad de una política liberal se han criticado posibles recortes se ha hecho una crítica también a la privatización de sanidad como antes he dicho con la mayor desigualdad social gizarte politikak

lehenengo aldiz en educación por ejemplo hemos pasado de dos mil seiscientos nueve millónes en el año dos mil dieciséis hace ahora dos años

en salud hemos pasado de tres mil cuatrocientos veintiuno millónes en dos mil dieciséis

en renta de garantía de ingresos en ayudas de emergencia social y en prestaciones de vivienda hemos pasado de cuatrocientos ochenta y cuatro millónes en dos mil dieciséis

es justo reivindicar nuestro modelo de renta de garantía de ingresos no hay ningún modelo equiparable en el estado y no aceptaré ningún ataque al modelo de cohesión social vasco aunque sí queremos mejorarlo y consolidarlo nuestro objetivo es claro evitar que se cronifique la situación de marginación social y reitero

un carácter temporal porque el objetivo ha de ser evitar que se cronifique la situación de marginación social entre determinados colectivos

tenemos que redoblar nuestra apuesta por la integración social y laboral y debemos mejorar la gestión sí hemos hecho propuestas concretas y nos gustaría

la tasa de pobreza por lo tanto en euskadi insisto catorce

la media europea veintitrés coma siete por ciento

europeo euskadi se sitúa entre los seis países europeos con menor desigualdad

francia o alemania el gasto en protección social en euskadi asciende a ocho mil quinientos euros por habitante por encima de la media europea que es de ocho mil y estos son datos públicos

de acuerdo pero aceptemos que estamos caminando en la buena dirección y aceptemos que estamos a la cabeza de europa se han citado las pensiones

institucionalmente y políticamente como institución estamos haciendo un esfuerzo para destinar recursos a las personas pensionistas que más lo necesitan un dato

sin recursos o con pensiones muy bajas recibieron en dos mil diecisiete una renta adicional que les ha permitido completar su pensión

estamos haciendo un esfuerzo con las personas jubiladas que más lo necesitan renta de garantía de ingresos para complementar las pensiones ayudas contra la pobreza energética

prestación complementaria de vivienda compensación al copago políticamente no hace falta que le recuerde de donde partió la iniciativa de garantizar este año y el siguiente la revalorización de las pensiones ratificada en este parlamento vasco

y a partir de ahí seamos rigurosos exijamos juntos la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social porque insisto también

tenemos programas de emprendimiento juvenil formación dual

becas con compromiso de contratación incentivamos la incorporación juvenil en las ofertas públicas de empleo en el primer año seis mil ochocientos jóvenes han logrado una primera experiencia laboral lo he dicho también esta mañana

que nuestros jóvenes siguen encadenando dos y tres contratos temporales al año y que sus sueldos tienen que mejorar y también es cierto que el paro juvenil

hasta el catorce coma nueve por ciento de este año según datos eustat

si tomamos en cambio los datos del instituto nacional de estadística en una edad

un año menor a la del eustat quince años a los veintinueve años

del veintiséis coma dos elevado sin duda pero muy por debajo del cincuenta por ciento que teníamos hace solo cuatro años y tenemos mucho recorrido de mejora

a toda la juventud vasca otra referencia crítica ha sido

ante lo que son las situaciones de empresas en crisis o en dificultades

zonas desfavorecidas bien saben ustedes señor hernández que ahora no está en el salón de sesiones

lo saben que estamos siguiendo la situación de la naval como seguimos la situación de cada una de las empresas que está en situación

porque son muchas las conversaciones que tenemos con ustedes para explicarles todo lo que estamos haciendo como gobierno todo lo que sabemos y todo lo que conocemos lo saben ustedes perfectamente desde el primer día hemos informado permanentemente ustedes lo saben

somos conscientes de la delicada situación que viven determinadas empresas y estamos cerca de su situación y la estamos siguiendo día a día mire si yo hiciera un repaso desde el tiempo que soy lehendakari desde el año dos mil doce hasta hoy cuantos han sido los plenos de control

podría ponerle ejemplos de demandas que se han hecho al gobierno vasco para el acercamiento a esas empresas

ante lo que era un mensaje alarmista y no quiero hacer la relación porque afortunadamente afortunadamente una mayoría muy

de entre todas ellas hoy está funcionando hoy está funcionando también somos conscientes del impacto de la crisis en zonas desfavorecidas especialmente en la margen izquierda las encartaciones y oarsoaldea y hemos

estamos finalizando un plan de choque industrial en esas zonas y he hecho mención a ello esta mañana también en colaboración con las diputaciones forales con los municipios vamos a trabajar para ofrecer una respuesta integral en materia de formación profesional vivienda y recuperación económica porque este es un compromiso compartido

le aclaro al señor alonso por alguna referencia que ha hecho en cuanto a la necesidad de una política liberal

cada vez más abierto al exterior nuestro índice de producción industrial crece por encima de la media de la economía vasca

tenemos empresas individuales que son líderes mundiales en sus mercados claro que tenemos que seguir mejorando y lo he dicho esta mañana en innovación especialmente

hacemos un seguimiento puntual también con todos los agentes que se destinan o destinan también sus esfuerzos

esta cultura de mayor empeño en la innovación hemos estado recientemente

y conocemos cuáles son los planes estratégicos para los dos próximos años también junto con innobasque claro que tenemos que afrontar el reto del tamaño empresarial

y trabajamos estrechamente con las empresas para ayudarles a superar estas y otras dificultades porque este es nuestro modelo de apoyo a la economía productiva

handiagotu egin da urtez urte tenemos un sistema público eficiente y de calidad y no acepto las criticas demagógicas que denuncian una estrategia de privatización de la privatización de la sanidad cuando lo que se quiere decir sin decir

en su caso la externalización de servicios no sanitarios no sanitarios y además no juzgados

mire primero estamos abriendo nuevos centros de salud públicos hemos abierto el hospital público de urduliz estamos ampliando los servicios públicos

y el veintidós de octubre abrimos el hospital público de eibar un dato

el departamento concierta solo solo el seis coma ocho por ciento de su presupuesto el seis coma ocho por ciento de su presupuesto es concertado sanidad pública sistema público universal

y reconozco la labor de las y de los profesionales de osakidetza la sanidad vasca es

de la federación por la defensa de la sanidad pública y creo que de esta federación participa también o de esta federación

de la defensa de la sanidad pública creo que se les hace cercano también este informe nos sitúa como la comunidad con menos días de espera quirúrgica

muy alejadas de otras comunidades por encima de los cien días seguimos trabajando diariamente para mejorar no obstante esta valoración ejemplos en estos seis meses

el plan de adicciones la interoperabilidad de la receta electrónica el banco de leche materna la ampliación de la subvención del copago farmacéutico a las personas con menos ingresos

hay un acuerdo en las bases de un acuerdo de educación que conduzca posteriormente a una nueva ley de educación la estrategia steam para incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas especialmente entre las mujeres jóvenes la iniciativa integral contra el acoso escolar la oferta pública de empleo con mil quinientos once plazas se ha puesto en marcha también el plan lector

y está iniciada esa reflexión entre los departamentos de educación y el departamento de cultura y política lingüística más ejemplos de avances a los que hemos podido llegar o alcanzar acuerdo sindical para la reducción de la interinidad y la cobertura de bajas desde el primer día esa acusación de falta de diálogo social acuerdo sindical para la reducción de la interinidad y la cobertura de bajas desde el primer día

en educación especial y en servicios de cocina y de limpieza acuerdos para dotar de mayor estabilidad

ejemplos también de lo que es el compromiso con la educación los cinco nuevos centros educativos como pueden ser los de gasteiz urduliz bergara y dos en bilbao

más de ciento noventa y tres obras de mejora de infraestructuras educativas más ejemplos

la formación universitaria dual en veintidós titulaciones universitarias hemos garantizado la equidad y tenemos que avanzar sí en excelencia pero atendamos también sí a los datos de pisa

atendamos y los estamos atendiendo y saben todas y todos ustedes que estamos en ese ejercicio pero atendamos también a lo que es luego

de todo lo que es la etapa de las personas estudiantes el número de estudiantes universitarios

tenemos que apostar también por el futuro de la cultura de la evaluación ya lo hemos puesto en marcha tenemos que invertir más y mejor la educación

inclusivo y de excelencia se ha citado la segregación y se ha planteado también un deseo de enfrentamiento entre lo público y lo concertado no voy a caer en ese terreno del enfrentamiento deseado entre lo público y lo concertado en todo caso diré con respecto a la segregación

el departamento de educación ya ultima nuevas acciones y decisiones que se añadirá al plan hablamos

o al departamento de educación hablamos de un profundo cambio en la realidad social del país no es un asunto que atañe solamente por lo tanto

en esta materia he sido muy claro estamos ante reivindicaciones justas y legítimas una nueva ley de igualdad y contra la violencia machista puede ser

desde la propia raíz que lo provoca es decir la desigualdad la violencia contra las mujeres es una lacra social que estamos comprometidos en erradicar

en métodos de análisis de riesgos y en establecer distintos niveles de protección

cuentan con un grupo específico encargado de la atención y seguimiento de los casos de violencia de género seguimos desarrollando nuevas herramientas para implementar la protección como la nueva aplicación para mujeres amenazadas con la app ciento doce

creo en una sociedad igualitaria y aporto también ya que se me ha

una reflexión sobre el alarde de hondarribia el gobierno vasco ha deplorado los incidentes agresiones e insultos y es necesario abrir reabrir insistir reinsistir

en los periodos de reflexión que se han venido trabajando en un nuevo periodo de reflexión que convoque a todas las partes para propiciar una salida en clave de convivencia igualdad y futuro

nuestra disposición a favorecer una solución dialogada lo hicimos en la legislatura pasada y lo hacemos también en esta legislatura y estamos dispuestos

nuestro compromiso es aprobar una estrategia integral el documento inicial está siendo contrastado y esperamos recibir las aportaciones de colectivos de mujeres y asociaciones

no es que nosotros lo estemos demorando es que estamos esperando

en este proceso de igualdad y equiparación entre mujeres y hombres permítame una referencia también a la familia

el reto de la demografía es fundamental y no estamos avanzando lo suficiente lo he dicho esta mañana también tenemos un acuerdo institucional un plan de familia pero además es crucial

y cierro todo este capítulo de intento de respuesta a las cuestiones que los grupos parlamentarios han planteado haciendo referencia a los comentarios relativos a la corrupción

se han citado determinados casos de corrupción que se están juzgando en los tribunales siempre he dicho que euskadi no es una isla

podemos caer en actuaciones irregulares y cometer delitos aquí como en cualquier otra parte lo diferente no es la actitud personal

y aquí se ha actuado desde el primer momento con transparencia

no se ha dado ningún tipo de cobertura a los casos que se han producido se ha puesto a disposición de los tribunales toda la información y el gobierno se persona

a la propia administración el compromiso de este gobierno y el mío personal es mantener el listón de la exigencia ética en el nivel más alto

referencia expresa a los problemas en la oferta pública de empleo

estamos poniendo todos los medios desde el viernes que fue la primera prueba pasado ese primer fin de semana

tanto interna como públicamente estamos poniendo todos los medios con toda diligencia y transparencia para qué para culminar la oferta pública de empleo con plenas garantías de igualdad de oportunidades ese es el objetivo

la oferta pública de empleo con plenas garantías d igualdad de oportunidades las personas que han participado en esta oferta pública de empleo merecen nuestras disculpas y sobre todo nuestro compromiso para garantizar la igualdad de oportunidades

todas las explicaciones y lo van a volver a hacer explicarán con detalle la investigación realizada y plantearán medidas de mejora de cara al futuro y lo harán en cuanto el parlamento fije la fecha por nosotros mañana mismo mañana mismo en cuanto el parlamento

hemos ofrecido una información completa y transparente tanto a los grupos parlamentarios a los grupos parlamentarios como al ararteko

por iniciativa propia por iniciativa propia

ha remitido a la fiscalía toda la documentación nuestra determinación es seguir colaborando con la fiscalía en todo lo que nos requiera y permítame poner en valor dos hechos

y sobre todo la calidad del servicio vasco de salud tenemos una sanidad con los más altos estándares que es patrimonio colectivo

bizikidetza eta giza eskubideen plana ere hemos propuesto un pacto social vasco para la migración conscientes de la necesidad de una respuesta compartida

cuatro centros de corta estancia y dos más de larga estancia lo hemos hecho en coordinación con todas las instituciones públicas y las entidades privadas

a todas las entidades privadas a todas a las que participan de las plataformas ciudadanas como también a todas las entidades privadas

en la coordinación en el esfuerzo de la coordinación en la atención a esta problemática una problemática muy diversa porque no estamos hablando solamente de inmigrantes en tránsito estamos hablando de refugiados estamos hablando de inmigrantes en tránsito estamos hablando de inmigrantes en situación de vulnerabilidad sean mujeres o sean niños

estamos hablando de todo ello y hemos hablado también con el gobierno español para lo que pueda ser también una delegación de la competencia de los permisos de asilo en las instituciones vascas

en las personas migrantes una nueva política penitenciaria es de justicia y no entiendo la actitud del partido popular muestran verdadera incapacidad de mirar al futuro y apostar por la normalización dela convivencia como saben todas y todos ustedes estamos trabajando y vamos a seguir perseverando porque la excepcionalidad de la política penitenciaria debe concluir definitivamente

avancen en la ponencia de memoria y convivencia en el necesario consenso para compartir una mirada crítica al pasado del terrorismo y la violencia eta honetan

y lo ha hecho de forma constructiva de forma constructiva y me parece bien pero no eluda una cuestión central y pendiente

crítica sincera y profunda de lo que eta ha supuesto para esta sociedad ustedes principalmente pueden hacerlo y son ustedes quienes tienen que hacerlo es necesario para la convivencia para la memoria y también para mejorar la situación de las personas presas azken atala autogobernua aurrena

y es una prioridad contemplada junto con los centros de prisiones señor alonso

y régimen económico de la seguridad social como las dos prioridades en nuestro programa de gobierno compartido entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y no diga que lo décimos con la boca pequeña cómo más lo podemos decir

más ante lo que fue el gobierno del señor rajoy cómo más ante lo que es el gobierno del partido socialista obrero español a quienes también política

como he dicho esta mañana la transferencia del régimen económico de la seguridad social insisto está en el estatuto

el programa y el problema de sostenibilidad del sistema es un hecho la gestión en euskadi es la mejor garantía de las pensiones futuras y en relación al futuro del autogobierno

en los nexos de la ponencia tal y como los he expresado esta mañana apelo a mantener la aspiración de ensanchar el acuerdo y comprendo y compruebo que hay acuerdo en ensanchar

en la fase jurídica es una nueva oportunidad para acercar posturas y avanzar en un proceso que volverá a este parlamento insisto en aprovechar la oportunidad del momento poner el foco en lo que nos une y avanzar en un acuerdo viable que tenga

cuando hablo de recorrido institucional me refiero a que recorrido institucional y viabilidad

me refiero a las cortes generales del estado para que sea después ratificado por la sociedad vasca abogo por lo tanto por más autogobierno y también

con el ánimo de clarificar también algunas cuestiones insisto en que un acuerdo ampliamente respaldado aquí en gasteiz tendrá una mayor potencia política cuando sea debatido en madrid que sí fuera el resultado de una exigua aunque formalmente suficiente mayoría en esta cámara

amplia mayoría tendremos mayor si se quiere decir así

para exigir que se nos respete allí donde somos minoría un amplio acuerdo es imprescindible no solo en su dimensión externa relativa a ganar una mayor legitimidad para negociar en madrid sino también y especialmente en clave interna de cohesión y convivencia armoniosa en la propia sociedad vasca o si se prefiere de la nación vasca y lo digo también a quienes han podido albergar alguna duda de lo que creo que claramente he dicho esta misma mañana en mi intervención acuerdo pacto cuántas veces me he referido

acuerdo entre vascos y pacto entre euskadi y españa

entre vascos en euskadi necesitamos acuerdos de amplio respaldo para fortalecernos como nación incluso con independencia de la actitud con la que nos encontremos

yo no sé si hay quien prefiere un choque con el estado del que resulte una frustración colectiva que un acuerdo integrador y

en cualquier caso nosotros queremos gestionar las ilusiones de este país y no sus frustraciones y sobre

a obstaculizar permanentemente con su capacidad de veto allí donde tiene mayoría el avance del autogobierno al ritmo que quiere la sociedad vasca

asistimos señor alonso a un incumplimiento estatutario que está desnaturalizando la particularidad jurídico constitucional del autogobierno vasco y nuestra capacidad de decisión

sobre las instituciones y sus respectivas competencias la constitución singulariza de forma expresa en su artículo dos

y el resto de comunidades autónomas a las que califica como regiones reconoce así señor alonso la constitución nuestra identidad singular histórica y de hecho instaura un sistema competencial diferenciado pero

el devenir del modelo en estos cuarenta años y reconózcase por favor ha quedado por un lado caracterizado como un proceso político normativo inacabado

y por otro desnaturalizado ya que se ha materializado una suerte de mutación del sistema competencial una minoración

el crecimiento orgánico del autogobierno vasco reconocido

entre centralización y descentralización en clave política y entre

no ha cesado nunca no ha cesado nunca el tribunal constitucional debía desempeñar el papel de árbitro y asegurar con su interpretación un equilibrio entre ambos polos pero ha ido inclinando indefectiblemente la balanza interpretativa hacia el binomio centralización

la paulatina degradación del autogobierno a través del cuestionamiento de los dos aspectos referidos ha sido a su vez consecuencia de un proceso involutivo cuya primera manifestación fue el denominado espíritu de la loapa la ley orgánica armonizadora del proceso autonómico

y a causa del irresponsable mercadeo político practicado con respecto al cumplimiento del estatuto cuyo resultado es una suerte de autogobierno flotante y sin garantías

el objetivo de una nueva redacción estatutaria compartida en euskadi acordada aquí en euskadi a mi modo de ver no puede ser otro que el reconocimiento como nación

con las consecuencias jurídico formales y relacionales que de ambas cuestiones

una relación con el estado basada preferentemente en la bilateralidad y el pacto lo he dicho esta mañana una capacidad competencial y de autorganización institucional singular

lo he dicho también esta mañana expresado de otra manera también diré

y como lehendakari nacionalista que un proyecto de autogobierno defendido y respaldado solamente o solo por la ciudadanía que vota nacionalista

no nacionalistas o no nacionalistas vascas sería mejor decirlo

de nosotros un fracaso estrepitoso de euskadi como comunidad nacional integrada y cohesionada en torno a unas cuestiones básicas y esenciales nuestra sociedad es plural y diversa como cualquier otra sociedad abierta y en nuestro caso

a otros ámbitos nacionales y estatales el pueblo vasco reconocido así en el estatuto de autonomía

el pueblo vasco que ha llegado hasta hoy es así y ahí reside su singularidad la pluralidad lingüística la pluralidad nacional

la voluntad de secesión existente en una parte de la ciudadanía son elementos constitutivos y constituyentes

respecto de otras comunidades políticas culturales y lingüísticas nuestro desafío también a mi entender el de todos pero especialmente en este caso si le sirve señor alonso

nuestro desafío especialmente el de los nacionalistas a quienes se supone un compromiso añadido por su patria

euskadi y que lo tenemos es defender ese pluralismo como factor esencial de nuestro ser político cultural y lingüístico y no soportarlo como una patología a eliminar mediante un proceso de homogeneización e uniformización por eso

sobre el autogobierno que en el fondo es un acuerdo sobre el modelo nacional posible de comunidad compartida debe ser necesariamente plural un acuerdo que reúna a diferentes es una posición legítima que debe valorarse también en términos de resultados de los contenidos de autogobierno

que puede suponer todo este debate el reto de la sociedad vasca para mí

punto es definir un proyecto de autogobierno que profundice en el actual que lo amplíe que lo mejore con ambición que suponga un paso más en la constitución de una

autogobernada con menor dependencia del estado entendido este como la expresión institucional del poder central un proyecto de

donde la relación de mayor igualdad y bilateralidad no se contemple como consecuencia de la transformación jurídica del estado bajo los parámetros de un estado de naturaleza solamente confederal porque sé y soy muy consciente de lo que supone también el riesgo

por eso mi apelación a la disposición adicional primera de la constitución por eso mi apelación a la disposición derogatoria de la constitución por eso mi apelación a la disposición adicional única del estatuto de gernika además de los artículos uno y dos del estatuto

articular un proyecto de autogobierno valiente ambicioso que tenga su defensa jurídica en el propio marco constitucional en base a una interpretación abierta

de los derechos históricos de un constitucionalismo o dentro de un constitucionalismo útil insisto

de la plurinacionalidad por los poderes del estado es clave para que el sistema de distribución territorial del poder político que mantiene enquistados viejos problemas derivados de la ausencia de una acomodación política a realidades nacionales como la vasca o la catalana logre superar este inagotado debate el esfuerzo para que la concordia y el sentido común vuelvan a presidir el ejercicio de la política

nuestro próximo gran reto también un reto que la gran mayoría de la sociedad vasca creo así espera que su clase política lidere y gestione con eficacia por lo tanto diré que el autogobierno

debe ser fruto o el fruto de un pacto entre los propios vascos un pacto que represente y refleje los fundamentos esenciales de la pluralidad vasca que el autogobierno vasco como pacto entre vascos diferentes tiene alcance estratégico que el proyecto de autogobierno debe ser viable jurídica y políticamente por ello tiene que ser un proyecto para ser negociado y aprobado con las instituciones con las cortes generales del estado

estatuto afianzando el poder contenido en el mismo

como se ha dicho el título de los derechos históricos y su engarce constitucional puede ser una vía fructífera no obstante

se entiende también a mi modo de ver que la pretensión de una persona soberanista llamen ustedes independentista

tiene que tener un cauce legal para poder materializarse si esa fuera la voluntad expresa de una mayoría clara de los vascos

convocada al efecto es lo que planteamos en europa ante la diversidad de realidades que se dan también en esta reivindicación

con el planteamiento de la directiva de claridad un modelo que sirva para todos los estados nación miembros de la unión europea que siendo estados complejos compuestos

como pueden ser la mayoritaria de la sociedad vasca de una consulta de una consulta que sea legal y pactada

el parlamento vasco puede realizar un pronunciamiento con el máximo acuerdo posible sobre el derecho de los vascos a ser consultados sobre la opción de la independencia en su caso o sobre cualquier otra siempre eso sí que previamente se haya trabajado también

yo creo que verificada la existencia de una mayoría clara de la sociedad vasca en su caso surgiría la obligación política y moral para las instituciones del estado de proceder

a las reformas constitucionales pertinentes para ofrecer el cauce legal a la voluntad mayoritariamente expresada se trataría y creo que esto lo podrán aceptar se trataría de recoger en un pronunciamiento solemne parlamentario

rubio llorente con motivo del conflicto político catalán en línea con la doctrina basada por el supremo por el caso de quebec

funtzionatzen du eta elkarrizketarako ateak zabalik ditugu europa sigue siendo la región más prospera y equilibrada del mundo

el progreso de europa se basa en el desarrollo regional y euskadi tiene que estar entre las regiones europeas que lideran la transformación social y económica y me sumo

que compareció aquí en el parlamento hace dos días que dice hay que reformar las instituciones hay que buscar un bien común global porque los países están cada vez más vinculados entre sí es necesaria una mayor integración económica y política vivimos un momento en que nuestras empresas y profesionales se enfrentan a un contexto global muy competitivo y cada vez más tecnológico

están liderando esa revolución cuatro punto cero y no se trata solo de avanzar consiste en avanzar en la buena dirección en el grupo de cabeza de europa y recupero la imagen que algunas veces ha utilizado el extinto oteiza y la trainera que mirando hacia el pasado

remando juntos tenemos experiencia y podemos avanzar remando juntos pongamos sobre la mesa prioridades y proyectos compartidos las puertas del gobierno están abiertas busquemos acuerdos

tengo ilusión por este país que crece y crea empleo solidario y abierto dinámico e innovador

que merece todo nuestro reconocimiento tengo ilusión por este país que aspira a crecer sin dejar a nadie atrás euskal gizarteak politika

y voy a tratar también de responder a las preguntas que usted me ha formulado puesto que me parece que tiene interés en que se la responda pero quiero decirle en primer lugar

también es mi patria y yo la siento como tal es nuestra patria españa es nuestra patria también gente que siente dos patrias gente que solo siente una yo no lo sé pero esos son nuestros son nuestros sentimientos pero es mi patria

es decir que si uno es nacionalista francés su compromiso con francia es mayor que si no es nacionalista francés es mayor el compromiso

por tanto aquí tampoco aquí tampoco o qué pasa qué visión es esa del país vasco qué compromiso hay que demostrar nosotros qué compromiso con el país vasco en defensa de sus libertades

con mis compañeros enterrados qué compromiso eso es querer a la patria

que es el compromiso de quien se juega su vida por aquello que ama que es la convivencia en euskadi

eso es lo que pone en riesgo porque vamos a la autodeterminación a la exclusión

eso es lo que se pone en riesgo y por tanto claro que soy patriota

lo que le pueda ocurrir a euskadi y me preocupa que entremos en una deriva que nos pueda llevar de la situación de enfrentamiento civil y de división social que estamos viendo en cataluña

yo no quiero eso para euskadi usted tampoco quiere eso para euskadi

lo que sea pero salga del laberinto no se deje atrapar por esas cosas que hace su grupo parlamentario yo lo que iba a parecer que le estaba convenciendo a usted de lo que ha hecho en la ponencia

no estaba con nosotros estaba con usted estaba convenciéndole pero hemos hecho toda la ponencia pero vaya lio ha metido

me pregunta qué ha cambiado desde el año pasado

y luego ha hecho otra broma que es hacerme la pregunta a mí de qué ha cambiado

de la casa del ahorcado el cuchillo de

yo le he hecho muchas preguntas usted me ha respondido con dos preguntas a la gallega

pero me ha respondido a la gallega de verdad me pregunta en serio que ha cambiado porque ha cambiado casi todo ha cambiado

de la realidad y por favor no me haga que quede yo como si fuera tonto

una cosa muy sorprendente que hay una nueva mayoría en madrid donde participan todos ustedes que todo el mundo además piensa que va a sacar algo usted treinta y siete transferencias estos señores

todo el mundo va a sacar algo todos menos el pp como es natural

oye y resulta que al único al que le pide el lehendakari el apoyo para los presupuestos de este año es al pp es que no lo entiendo al único

y tuviera que entrar en la cámara con capirote negacionista

político evidente le voy a decir una cosa para mí lo importante es lo que yo le dije porque me ha preguntado cuál es su política

y que le iba a garantizar una mayoría para que pudiera funcionar y hacer reformas en euskadi si no se iba con los radicales y lo que ha cambiado es que usted ha pactado lo más importante que hay

ha pactado el derecho de autodeterminación está ahí y mientras eso sea así nos ha cerrado la puerta mire yo voy a traer una proposición a este parlamento para enmendarlo yo le pido que la vote

y entonces hablamos no sé si la tendrá que votar rompiendo la disciplina de su grupo pero vótela y hablamos

porque yo no soy compatible se lo hemos dicho muchas veces

usted tiene una visión tan benéfica de usted mismo que piensa que sus presupuestos son tan buenos que

y sí yo digo hemos hecho unos presupuestos entre el partido comunista y yo que nos han salido fenomenal

entonces yo creo que vamos a ser serios se lo digo siempre en un tono para que ustedes puedan reírse y disfrutar pero se lo digo muy en serio qué ha cambiado que se ha nublado señor lehendakari se ha nublado

pero puede llover y por tanto si no hay un cambio otra vez a volver a la situación que teníamos pues es muy difícil que usted pueda encontrar colaboración

porque no quiere que ningún otro le apruebe los presupuestos y ningún otro tampoco se los quiere aprobar

solo quiero que no meta a euskadi en aventuras y que no me lleve a pactos que son impresentables en torno

como el partido popular y que además usted ha calificado

y por tanto en situación de fracaso estrepitoso la colaboración con el pp se hace muy difícil porque nosotros no deseamos ese fracaso para el conjunto

con las barbas del vecino en fin hay muchos problemas pero no tengo mucho tiempo tengo dos minutos y quiero hacer un aprecio al señor egibar y yo se lo he dicho si rompe con bildu podemos hablar de ahí pues hay un futuro presupuestos rgi

una política que beneficie al conjunto de los vascos mientras tanto pues la cosa como comprenderá para mí es muy difícil yo he visto al señor egibar que me ha gustado la intervención porque me ha recordado mucho

cuando se pregunta oiga y los romanos qué han hecho por nosotros los romanos

y en qué perjudica esto qué perjudica que no haya qué puede cambiar claro que han hecho los españoles por nosotros ha hecho usted un discurso que le encanta a usted didáctico pedagógico para decirnos básicamente que españa sobra

pero qué ha hecho por nosotros españa y dice uno pues nos paga las pensiones

y qué más ha hecho españa por nosotros qué más hace españa por nosotros además de pagarnos las pensiones hombre está el ave

y europa si no estamos en españa no estamos en la unión europea

no claro dice en la liga de futbol bueno bien vale quitando las pensiones

europa y la liga de futbol qué más ha hecho españa por nosotros bueno yo les diría no les va a gustar está la guardia civil

españa hace muchas cosas por nosotros y esto parece una broma pero se lo voy a decir muy en serio

cualquier referencia con decir no pasa nada por ser independiente no pasa nada porque vamos a seguir respetando

yo le digo nosotros somos españoles en euskadi no se entiende el país vasco sin españa

juntos somos más fuertes romper dividir no nos lleva a ninguna parte yo me pregunto muchas veces y lo he hablado con usted y yo me gusta escucharle para ver si puedo adivinar

en el siglo veintiuno los nacionalistas quieren la independencia o no y si no quieren la independencia entonces no son nacionalistas y

qué es una estación intermedia una estación intermedia es una estación intermedia hacia dónde hacia una liquidación progresiva de todo lo que tenga referencia o sabor a españa en el país vasco no

sí como comprenderá yo no puedo ser partícipe

empobrece y no representa lo que es la pluralidad y el sentimiento mayoritario a pesar de los votos

de los socialistas con la sociedad vasca con su pluralidad y con su progreso porque reconocer la pluralidad de la sociedad vasca para el progreso del conjunto de euskadi y tiene que ser la base también para lograr los acuerdos porque el acuerdo por ejemplo que sustenta este gobierno tiene

y otra que no tome ningún acuerdo que enfrente

y también quiero reiterar el compromiso socialista con los acuerdos firmados desde la mutua lealtad y el compromiso para ampliar esos acuerdos sin poner en riesgo lo conquistado hasta ahora con el estatuto de gernika

y por eso no vimos con preocupación el inicio de esta legislatura porque ya sabíamos que estábamos en minoría y pusimos en valor la necesidad de acordar entre todos los grupos

de las cosas que nos unen a todos pero la verdad es que aún sabiendo que estábamos en minoría y aun habiendo escuchado los discursos de trazo grueso que hemos escuchado muchas veces en este parlamento a los grupos de la oposición lo cierto es que esta mitad de legislatura se ha saldado con amplios acuerdos y eso debe seguir siendo el acicate de todos nosotros y nosotras en esta cámara

y desde luego señor alonso acuerdos sin vetos cruzados porque nosotros no cerramos la puerta ni al partido popular ni a bildu ni a elkarrekin podemos a ningún grupo de la cámara estamos abiertos a todos y ustedes tampoco se cierran a los acuerdos con el resto de grupos

han acordado como una treintena de veces más o menos con el resto de grupos con bildu y con podemos acuerdos simplemente por zurrar al gobierno

luego es una suma de bloqueo que ustedes eligen los grupos de la oposición en ocasiones

que construyen país y luego también se ha puesto de manifiesto que ustedes tienen cuentas pendientes con el pnv

consecuencias parece ser pero yo le voy a dar un dato y le voy a recordar una fecha el pasado veintitrés de mayo el pasado veintitrés de mayo a la mañana en este parlamento el pnv y bildu acordaban unas base soberanistas para reformar nuestro autogobierno

ustedes unían sus votos a los del partido nacionalista vasco en el congreso para sacar adelante los presupuestos y así conseguir mantener

impedimento como para no seguir acordando con el gobierno vasco presupuestos

o planes del gobierno por lo tanto la mano tendida para acordar al grupo popular y al conjunto de los grupos de la cámara eta

el pnv y nosotros dos proyectos de futuro muy diferentes

en la que solo caben los nacionales luego estamos las minorías que encima ya no somos tan vascos y luego ustedes a partir de ese concepto de nación construyen las instituciones

a todos por igual que suman y a partir de ahí ordenamos nuestras competencias y nuestros poderes eta gainera gero entzun dizut gauzatxo bat eta

dauzkate eskubideak ez herria y nos invitan al acuerdo aquí hemos escuchado muchas invitaciones al acuerdo

no hay acuerdo posible así que aquí o comulgamos con el dogma de fe nacionalista o no hay posibilidades de acuerdo y luego usted ha mencionado

le parece bien o mal esa ley parece molestarles en otros sitios

y esta ley fundamentalmente regula dos cuestiones fundamentales una la posibilidad de tener una hacienda propia como tenemos nosotros

e histórico y contiene un elemento sustancial que es su compromiso con el proyecto común de españa y su desarrollo dentro del marco constitucional

me gustaría que usted pudiera aprovechar su turno para aclararme algunas cuestiones solo le voy a plantear dos

eso que ustedes llaman la legitimidad democrática qué quieren decir exactamente que solo van a cumplir aquellas leyes que les gustan como está pasando en cataluña como hacen sus compañeros de cataluña porque tienen la mayoría

porque eso acaba con la pluralidad y con la convivencia de este país y luego otra cuestión que es muy relevante cuando hablan de reconocer por ley la nacionalidad qué objetivos persiguen al hacer este ley porque entiendo que harán una ley para dotar de derechos diferentes

si vamos a tener los mismos derechos luego en el fondo ustedes están creando una distinción con distintos derechos y dos tipos de ciudadanos y luego

porque en el pacto del setenta y nueve que hicimos ustedes y nosotros su forma de cambiarlo

no es un veto está en el estatuto de gernika y nosotros respetamos lo que pactamos los socialistas vamos a defender siempre ampliar

y no nos vamos a convertir en nacionalistas ni nosotros les queremos pedir a ustedes que dejen de ser nacionalistas pero tenemos que ser conscientes que el nuevo estatuto tiene que dar cobijo a todos a los nacionalistas y a los no nacionalistas tiene que servir por lo menos para las próximas generaciones

que entremos todos en el marco porque es nuestro marco de convivencia y que seamos libres de seguir pensando como queramos y a bildu la verdad es que no tengo ninguna duda de su posición en el autogobierno no porque

pero sí le quiero decir una cosa señora iriarte los socialistas

y le diré más preferiríamos que utilizara los escaños en beneficio de todos los ciudadanos y no solo de los nacionales

que podemos acordar cosas porque lo hicimos en el pasado la legislatura pasada conseguimos un derecho nuevo para los ciudadanos vascos el derecho a la vivienda y lo hicimos ustedes y nosotros y creo que en esta legislatura tenemos retos como por ejemplo la reforma de la renta de garantía de ingresos o acordar unos presupuestos que aprovechen los mayores recursos que hemos tenido

para dotar de más inversiones y nuevos servicios públicos a la ciudadanía porque tenemos una fiscalidad ahora más progresiva y más efectiva y se equivocaron

hablaban solo de subir o bajar tipos nominales porque nosotros pusimos el acento en lo que es verdaderamente importante cómo conseguimos más recursos haciendo que paguen más quienes más ingresan y eso la prueba de que eso ha funcionado son los recursos que ahora estamos consiguiendo a través de nuestras haciendas forales con esta fiscalidad

así que ahora vamos a ver si todos los que nos sentamos en esta cámara somos capaces de acordar cómo utilizamos esos recursos de más que hemos conseguido gracias a la reforma fiscal en beneficio

y la verdad es que señor martínez tenía ganas de que llegara este debate para ver cómo se aplican ustedes el cuento de lo que piden a los demás porque esperaba que se repartiera el tiempo con alguna compañero suya de bancada por ejemplo por criterios de paridad que no porque ustedes van dando clases a los demás partidos y a los demás grupos parlamentarios y yo es simplemente por aportarle el dato porque la humildad también está muy bien y que conste que no dudo de su compromiso feminista en absoluto pero entra dentro de las contradicciones en las que a veces su grupo

usted no deja de repetir y su grupo que ustedes son la izquierda vasca igual también les hace falta repetir continuamente lo de que son la izquierda porque precisamente acudieron a las últimas elecciones diciendo eso de que la izquierda y la derecha

y por lo tanto ustedes necesitan repetírselo a sí mismos para convencerse de que son izquierda pero sí le voy a decir una cosa la seña de identidad de la izquierda fundamental

en los dos años que ustedes llevan en esta cámara qué han hecho por mejorar la vida de una sola persona en euskadi

con el tema de lo nacional y no nacional porque fueron a campaña defendiendo el derecho a decidir los nacionalistas les tomaron la palabra y la mano

en ese lío constante pero han pedido a los expertos que salvaguarden la ortodoxia de las bases nacionalistas porque ese texto que ustedes

justo por todo lo contrario es un papel mojado porque no tiene ninguna viabilidad y nosotros vamos a seguir trabajando por una reforma que consolide derechos y que sea viable porque los socialistas hemos sido la garantía para la ciudadanía vasca en estos ciento treinta y dos años para avanzar en derechos y libertades

soberanista así que yo creo que tenemos un curso por delante en el que tenemos todos la capacidad

yo ofrezco la mano tendida de mi grupo para debatir y acordar en beneficio de todos los ciudadanos

y también el de pactar una forma de seguir viviendo juntos
y respetándonos nuestra diferencias eskerrik asko eskerrik asko mendia

que asistir un año más a un debate en este parlamento en el que el guion se repite como el día de la marmota todos los años

nos intenta convencer a su manera de la suerte que tenemos

la cosa no cuela porque es evidente que la acción del gobierno está inflada es evidente que se venden logros vacíos es evidente que la mitad de las cosas que se presentan son simples titulares

arreglan nada no dan respuesta de las necesidades de ciudadanía que hemos planteado antes y para hacer digerible todo esto en algún momento en algún susurro fugaz e inaudible el lehendakari viene a decir algo así como que

y después además para compensar todo esto sale el señor egibar pero claro para compensar dice cosas que se parecen lo que una castaña a un huevo en lo que dice el lehendakari especialmente en autogobierno

no cuadra señor lehendakari toda su oferta de diálogo la acaba de dinamitar una vez más y van ya unos cuantos meses el señor egibar

es que son músicas enfrentadas con quién nos quedamos con quién hablamos con usted con el señor egibar pluralidad y pragmatismo o maximalismo

nos apartaría hoy de lo que nos interesa que es que en este debate se hable de la ciudadanía vasca

no vamos a caer en el error de que una vez más el autogobierno planteado además en términos de confrontación

que tiene la ciudadanía vasca el gobierno está contentísimo de que no se hable de las políticas de vivienda de que los precios de alquiler están disparados

para no tener que dar explicaciones sobre las políticas de empleo a pesar de que la precariedad

usted se maravilla de poder pasar de puntillas por la situación de la naval y luego entrar un poquito a eso que corre el riesgo real de bajar la persiana o de que no se evidencia la incapaz de diálogo de este gobierno

el gobierno que ha roto el diálogo con los sindicatos presume de su compromiso el mismo gobierno

hablando de diálogo el departamento de desarrollo económico nunca

con este grupo parlamentario para informar de ninguna empresa y desde luego mucho menos de la naval tres recursos a la mesa de este parlamento hemos tenido que introducir por información denegada inaudito inaudito

en minoría parlamentaria sin apoyos para sacar los presupuestos

con un fraude masivo en las ope de osakidetza con un montón de problemas sociales que están ahí

ustedes quieren hacer creer además a la ciudadanía que la única euskadi posible es la que ustedes proponen y hoy es más necesario que nunca soñar y hacer realidad una euskadi mejor señor lehendakari me ha preguntado si soy humilde

perfectamente consciente yo no gobierno

es usted el que no resuelve los problemas es usted y el que tendría que ser humilde es usted trata de atacar al mensajero

muy poco eficaz la realidad es que yo hoy

señalar sus fracasos lo que hace mal su gobierno y lo que hace falta por hacer usted no usted es gobierno

que no es capaz de resolver problemas reales que sabe que son ciertos y a pesar de todo esto que ustedes nos reprochan a pesar de que nos dijo anteayer la misma señora tapia en elkarrekin podemos

por eso en el nuevo curso ustedes tendrán que decir sí o no a nuestras propuestas

mendia que nos ha dirigido una pregunta directa sobre este tema

con propuesta como la de un plan de reducción de las horas extras ilegales

pueda perseguirlo impulsar el mayor plan de empleo de nuestra historia incidiendo en el ámbito de los cuidados el empleo verde y orientado a las comarcas más castigadas por el paro como ezkerraldea

propuestas en vivienda como exigir la retirada del recurso del gobierno central contra la ley de vivienda orientar el cien por ciento de los recursos de las políticas públicas de vivienda al alquiler adoptar medidas fiscales para movilizar

de viviendas vacías en juventud aprobar

es iniciativa de este grupo en economía revertir la reforma fiscal pactada con el partido popular el año pasado y equiparar el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital

en concurso de acreedores que no son económicamente viables tomar el control público de la naval

de la economía vasca como es el sector naval en educación

aprobar una ley vasca de educación pública que ponga en el centro desde el sistema las necesidades de cada alumno o alumna diseñar un plan de construcciones y mejoras

espacios educativos adaptados para las necesidades del alumnado en euskera asegurar la gratuidad del estudio de euskera hasta conseguir

dar reconocimiento a los niveles iniciales de a uno y a dos en salud reducir las listas de espera en atención primaria aumentando la dotación presupuestaria y de recursos humanos ampliar las prestaciones de osakidetza podología y odontología

de servicios privatización en medio ambiente aprobar de una vez por todas

aprobar una nueva ley vasca de protección de los animales y reducir

la dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles igualdad y violencias machistas poner en marcha un acuerdo parlamentario que se logró a iniciativa de nuestro grupo para mejorar y ampliar el acceso a apoyos económicos de las mujeres víctimas de violencias

e hijas incremento del presupuesto de las instituciones vascas que dedican a igualdad para que alcance los veinticinco euros per cápita en dos mil diecinueve

de víctimas de violencias machistas otra iniciativa también de mi grupo

en inclusión social bajar la edad de acceso a la rgi a dieciocho años revertir los recortes sobre la cuantía de la rgi y condiciones de acceso que impusieron

elaborar de forma participativa con el tejido asociativo la estrategia integral de lucha contra la pobreza

a iniciativa de nuestro grupo también y que su gobierno tiene en un cajón a todas estas cuestiones tendrán que decir que sí o que no en este año y sobre la corrupción que salpica a su gobierno señor lehendakari presume de su exigencia épica desde luego exigencia judicial no judicial ninguna ustedes

tampoco han pedido pena para los corruptos más trigo y menos predicar y con las ope

exigencia ética lo dudo negaron el caso

negaron el caso recuerda cómo han perseguido a las denunciantes recuerda cómo no hay ni un solo acusado cuatro meses después ni un acusado

sus presupuestos y también llaman a nuestra puerta nuestra respuesta es clara

quieren acordar los presupuestos ya saben lo que les vamos a plantear me acaban de escuchar medidas como las que acabo de citar y muchas otras si quieren nuestro apoyo su gobierno tiene que dar
un giro total no vamos a ser el sostén de sus políticas isiltasuna mesedez señor egibar escuchándole me ha recordado

que se confundía cuando culpaba a la oposición de que el gobierno

son ustedes lo que tienen que moverse y acercarse al resto y créame que visto lo de hoy el trecho que tienen por delante es

somos capaces de llegar a acuerdos lo hemos demostrado recientemente y estamos trabajando en ello con el gobierno de pedro sánchez pero acuerdos con contenidos sociales

el precio de la vivienda para subir el salario mínimo interprofesional para mejorar las pensiones para que la juventud tenga oportunidades y eso mismo

serias y posibles y hasta el momento la única respuesta que hemos obtenido de su gobierno es atacar

una vieja estrategia que le retrata señor lehendakari ya que le gusta tanto la trainera y le gusta remar haga una ciaboga
y entonces podremos remar eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

politika egitea zuk esan duzu adibidez los jóvenes necesitan o les traslado mi aliento a los jóvenes

prorrogar los presupuestos pero desde luego no es un buen dato en la cuenta de resultados de un gobierno

estamos viendo un iceberg y queremos saber de qué tamaño

queremos saber si es la excepción o si es la regla y le hablo

hiriko y como todos los demás casos en los que altos cargos de la administración

como le he dicho antes como mínimo éticamente queremos saber si es la excepción a la regla

cuya parte de abajo no sabemos qué magnitud tiene queremos saber eso claramente porque será importante para que en este país no se instale que en euskal herria también hay corrupción o hay chanchullos o hay enchufismo

ampliando y calando en toda la ciudadanía estatusaren inguruan lehenengo eta behin

en verdad y dogma de fe el último me parece que el de la inmaculada concepción en la iglesia católica pero ya sabe usted que está

el marco que ustedes nos quieren imponer nos excluye

no veten el acuerdo que hemos acordado en la ponencia de autogobierno akordio on bat da eta etorkizunerako oinarriak jartzen dituen akordio bat da

ezinbestekoa den akordio bat da eta zuri urkullu jauna ez dakit oso ondo ulertu dizudan pero no sé si me está diciendo que el pp y el psoe tienen derecho a veto en esta historia no

no lo tienen verdad pues que no lo tengan porque creo que cuando hablamos de mayorías hablamos de mayorías que este es un acuerdo al que se pueden abrir tanto el partido socialista como elkarrekin podemos que

euskal herria bildu siempre ha tenido la mano tendida para que eso sucediera así y que desde luego si ellas y ellos quieren este acuerdo estas fases acordadas podrán tener nuevos socios y nuevas socias para que entre todos podamos hacer una ley que ni tan siquiera así probablemente pueda tener recorrido institucional

adelante porque entonces la alternativa cuál es señor urkullu cuál es la alternativa

lo tendría no lo sabemos como no sabemos si este lo tendrá o no

intentando que efectivamente podamos tener una relación de igual a igual con el estado español y que lo que se haya acordado en este parlamento en esta parlamento que hacemos las leyes las leyes las hacemos aquí las leyes se deberían de respetar las leyes que hacemos aquí y

español porque si no pues tendremos que hacer otro camino no sé por qué resopla señor

el señor alonso yo el lio que tiene de patrias no se lo puedo resolver

eso de que se sienta patriota vasco y español etcétera etcétera no le puedo resolver

de lo que pueden ser bases o no democráticas también ha hablado la señora mendia de lo que pueden ser derechos individuales o colectivos

si se leen las bases las bases ustedes las califican de soberanistas despectivamente

divisor retrógrado no no son bases democráticas democráticas que sí aluden a un sujeto político que es el pueblo vasco

y como tal sujeto si se habla de en virtud de su nacionalidad o en el proyecto original

como expresión de su realidad nacional hay nación o no hay nación hay estado plurinacional o no hay o es estado unitario único indivisible indisoluble de qué estamos hablando porque a partir de ahí es que la pista la ha dado usted señor alonso

a mi interpelación constante y usted ha querido decir en qué nos ha perjudicado españa

pero en términos de autogobierno cuando ustedes hablan de

y cómo lo blindamos estamos hablando de esas competencias que hacen que las instituciones vascas puedan afrontar de mejor manera los desafíos y la solución a los problemas que tiene la ciudadanía estamos hablando de eso

el que tengamos competencias plenas en materias socio laboral claro la contestación es en nada beneficia

gestionar directamente ámbitos bien sean de sobre infraestructuras sociales culturales

los temas que nos afectan en qué perjudica a los vascos eso que se dice y que ustedes han bautizado como base soberanista y esto es retroceso es una involución no no eso es una falacia

porque todo el mundo sabe sea de adscripción nacionalista no nacionalista o la que sea sabe que las instituciones vascas gestionando desde la cercanía todos los temas que hasta ahora han podido ser transferidos se gestiona directamente y se gestiona mejor se gestiona

eso es así y ustedes quieren vender la otra falacia de que este país no necesita más porque

hori da y estamos estableciendo además desde esa perspectiva de bases democráticas un vínculo con el estado un vínculo con el estado vamos a tener relación con el estado según esa formulación según esa formulación es que la convivencia no se puede imponer

la convivencia no se puede imponer tampoco en el orden personal no se puede imponer y menos con violencia la convivencia entre los pueblos también hay que pactarla y lo que salga o lo que surja de aquí que tendrá un recorrido institucional

cada vez que va menguando la fuerza electoral respectiva en este caso constitucionalismo español psoe partido obrero español partido popular ciudadanos ni existe va subiendo va incrementando

porque la reforma estatutaria la puede promover el gobierno español si quiere quince parlamentarios pero para que pueda tener la aprobación ya no vale la mayoría absoluta en el famoso voto particular del partido socialista

ya se mete una mayoría cualificada no son suficientes treinta y ocho ya son cincuenta para arrancar eso por qué es es un acuerdo imagínese una suma

y es más democrático que el que suma cuarenta y seis o qué es que el hecho de que esté eh bildu le resta sustrato democrático a un acuerdo

es cristalizar el proyecto independentista de autodeterminación de los que asesinaban o como dice del burgo no tienen validez los votos de eh bildu y por qué si estamos un proyecto para todos

al conjunto de la ciudadanía por qué esta exigencia de vetos y cuando estamos hablando de identidades no es un debate que nos deba preocupar a nadie porque señora mendia a ver si estamos hablando de estado plurinacional

conoce usted alguna nacionalidad sin nacionales me puede decir

sin embargo es evidente para que las identidades los sentidos de pertenencia que se dan en este pueblo

en igualdad de condiciones de eso se trata y eso ya se debatirá cuando proceda pero no le resten

a lo que son bases en este momento ya depositadas en este parlamento que no son de ninguna formación política jarraituz

intervención cruzada de preguntas y demás yo digo bueno ensanchar las bases las mismas las propias no

ensanchando por supuesto y veremos exactamente qué recorrido institucional tiene pero aquí según la reforma del estatuto el artículo cuarenta y seis

es que tenga un refrendo ciudadano superior al que obtuvo al que ustedes votaron que no sus anteriores ustedes son

votó que no y estos se abstuvieron

con la abstención que ellos hubieran proclamado bueno ea no

un lio esto obtuvieron un cuarenta y uno por ciento de abstención pero el estatuto de autonomía tuvo un cincuenta y tres coma cuatro de aceptación sobre censo hay que superar eso

con las fuerzas políticas que actualmente avalan esas bases más podemos aunque sea parcialmente pero ya veremos en qué termina y el partido socialista y ojalá el partido popular que podemos superar ese cincuenta y tres por ciento por qué no lo vamos a superar por qué no los vamos a superar pero bueno aceptemos

que son unas bases democráticas eta amaitu nahi nuke gainera kontu batekin que viene también a cuenta con lo de la participación en la política ya sé que lo han reproducido por ahí

señora mayor que asistía a la diada del once de septiembre en barcelona

sí luchamos podemos perder si no luchamos perdemos seguro por eso estamos aquí y eso significa también

avanzar crecer mejorar por una sociedad más justa en euskadi